buenos días a todas las parlamentarias hoy nos toca volver a debatir sobre la prevención de la violencia en el deporte

en el último pleno de control la indefinición y la falta de concreción fueron la tónica general en las respuestas que obtuvimos

la ausencia de actividad de un órgano que en teoría debería ser una herramienta útil y efectiva para erradicar la violencia en el deporte en euskadi

en la intervención del señor zupiria las razones y los motivos

vasco contra la violencia en el deporte kirolalde no tiene actividad cuando a todas luces es un órgano útil y efectivo para el impulso y elaboración de medidas de prevención

de todas las representantes y agentes del ámbito deportivo vasco sin embargo la realidad es muy distinta se desconoce cuándo se reunió por última vez

no consta ningún tipo de actividad desde dos mil doce y no se ha publicado ninguna memoria anual desde dos mil once se trata en definitiva de un órgano fantasma abandonado por los dos últimos gobiernos vascos ambos liderados por el señor
urkullu como lehendakari los episodios de violencia mesedez

que tienen lugar al albor de algunos eventos deportivos relacionados con el fútbol masculino de alta competición son una realidad contrastada

que se habían producido en los últimos años en las tres capitales vascas cuatro de ellos se produjeron en el transcurso de esta legislatura cinco si contamos con lo ocurrido ayer solo en el último año

han sido varias las ocasiones en las que se han producido importantes incidentes

en euskadi nos preocupa y nos preocupa mucho el incremento exponencial de las exaltaciones de odio y violencia

y específicamente en el ámbito del fútbol masculino de alta competición y ayer mismo sin ir más lejos durante el transcurso del partido que disputados en san mamés el athletic de bilbao

volvimos a ser testigos de agresiones y comportamientos violentos es vergonzoso

utilice los eventos deportivos para dar rienda suelta a sus frustraciones y a la rivalidad mal entendida con la excusa del fútbol masculino los incidentes de ayer

uno de los cuales presentaba un corte en el cuello además algo tuvo que fallar cuando dentro del propio campo de fútbol varios ultras consiguieron introducir bengalas

que habían acudido a ver un simple partido de fútbol hay que añadir también que uno de los ultras

por agredir y lanzar sillas contra agentes en un partido que enfrentaba

nos preguntamos qué tipo de medidas preventivas permiten que un individuo así continúe teniendo acceso a campos de fútbol

de alto nivel y sus beneficios e intereses económicos parecen estar por encima

a disfrutar de los aspectos positivos de acudir a un evento deportivo esta situación es insostenible y desde elkarrekin podemos entendemos

para iniciar una profunda reflexión y tomar medidas eficaces e iniciativas que puedan ser ejemplares ante la sociedad para desterrar de esta forma de los espacios deportivos

los diferentes agentes presidentes de clubs implicados en los episodios de violencia o de la propia federación de fútbol han indicado que hay que endurecer las medidas y abordar el problema de la violencia en el deporte

o disfrutan como aficionadas el fútbol en este caso y por supuesto la implicación y coordinación de las instituciones y de las medidas que se impulsen desde el consejo

en el deporte kirolalde y desde elkarrekin podemos entendemos que esa reflexión hay que realizarla también desde la dirección de actividad física y deporte

la prevención de este tipo de fenómenos es fundamental hemos defendido en otras intervenciones

y la actividad física como fuente de salud integración cooperación y superación que facilite la cohesión social y sirva como herramienta para la lucha contra la desigualdad la violencia la exclusión o la rivalidad mal entendida para ello es imprescindible la adopción de estrategias de prevención

de exclusión de todo tipo de violencia en torno al deporte y más dentro del deporte profesional

de los partidos de futbol y el deporte de masas por excelencia es referencia y ejemplo ante los ojos de la ciudadanía terminábamos nuestra intervención del otro día reclamando que acudir a un partido de fútbol masculino de alta competición o a cualquier otro evento deportivo debería ser una experiencia saludable enriquecedora y segura donde el deporte la superación la inclusión la cooperación y el juego en sí mismo sean los verdaderos protagonistas y la violencia y sus diferentes manifestaciones queden excluidas completamente y es desde este punto del que partimos para elaborar la moción que hemos presentado

finalmente hemos llegado a un acuerdo con eh bildu para presentar una enmienda de transacción conjunta este parlamento tiene que manifestar su rechazo a toda actitud y comportamiento violento que se comete con la excusa del deporte tanto el que se practica en el deporte base como en el de élite o de alta competición

en torno al fútbol profesional masculino tenemos que ser capaces de reivindicar los aspectos positivos saludables y enriquecedores tanto de practicar como de disfrutar

en nuestra comunidad autónoma y tenemos que hacerlo como ya hemos dicho antes elaborando estrategias de prevención y contando con la colaboración y coordinación de todos los agentes implicados la participación activa de instituciones asociaciones y entes deportivos es imprescindible para trabajar la premisa de que la violencia en el deporte no deja de ser

en la sociedad en general es un problema de todas que solo podremos combatir entre todas

son herramientas imprescindibles y muy necesarias el órgano del gobierno vasco

kirolalde un instrumento participativo para el estudio y prevención de las diferentes modalidades de violencia del deporte sin embargo como ya quedó demostrado en nuestra interpelación

campañas y acciones para conseguir que la violencia no sea la noticia

de los eventos deportivos en euskadi y más concretamente en el fútbol masculino de alta competición pedimos desde elkarrekin podemos que se active y potencie esta herramienta

al que pertenece el consejo vasco contra la violencia en el deporte es realizar un diagnóstico de la situación y comenzar por elaborar un estudio detallado sobre las características evolución causas y consecuencias de la violencia en el deporte en especial teniendo en cuenta los últimos episodios de violencia al fútbol profesional masculino así como un plan integral de choque contra la violencia en el deporte que incorpore medidas eficaces tanto en relación con la prevención

deberán ser presentados en la comisión de cultura euskera y deporte para su debate en profundidad a todas luces no estamos reclamando nada raro en euskadi hay una realidad en la que los incidentes de violencia en acontecimientos deportivos van en aumento y es necesario

ni se ha impulsado la actividad de kirolalde ni se ha renovado la composición del comité ni se han tomado medidas eficaces contra la violencia en el deporte peor aún no se nos ha dado ninguna explicación en esta cámara de los motivos y razones por los que el consejo vasco contra la violencia en el deporte no funciona tras la mala gestión llevada a cabo por el consejero a pesar que durante su ejercicio como consejero el señor zupiria

se han producido al menos cuatro casos graves de incidentes en torno a partidos de futbol profesional masculino cinco con el ocurrido ayer

de alta competición en particular deben abrir una profunda reflexión en torno a si es aceptable que grupos ultras sigan formando parte de su afición

y comportamientos violentos deben tomarse medidas disciplinarias internas permanentes es inaceptable

para desarrollar comportamientos y actitudes violentas no sea sometido a medidas ejemplares pongámonos a trabajar para prevenir y erradicar la violencia en el deporte en euskadi
tenemos las herramientas y solo nos falta la voluntad política mila esker eskerrik asko garcía

bien mi grupo después de los sucesos del pasado día en bilbao después del

spartak quiso hacer una cosa quiso trasladar con la proposición no de ley que presentamos al día siguiente

el debate sobre la violencia en el deporte al parlamento vasco

en el doble ámbito seguramente y como se verá en este pleno

se tratará pero en el ámbito de lo estrictamente deportivo y de las competencias y del debate político que podemos tener también en esta cámara

en relación con la violencia en el deporte ese fue el suceso desencadénate pero lógicamente

al ámbito de lo deportivo y de determinadas conclusiones y análisis y posibilidades que nosotros en esta cámara como analizamos tantas otras cuestiones porque forman parte de nuestras competencias y de las competencias sin duda del gobierno vasco nosotros esa pretensión la hemos conseguido puesto que la enmienda de transacción que hemos firmado hemos logrado implicar al gobierno vasco

de un documento como comunicación que será trasladado a este parlamento vasco y que debatiremos sin ninguna duda en la comisión de cultura y deportes nosotros también estamos de acuerdo con

de la enmienda de transacción de la señora garcía yo creo que

un esfuerzo de transacción definitiva en torno a nuestra proposición no de ley en torno a su moción en torno a las enmiendas

que no va a ser posible pero en cualquier caso también digo que el fin que nosotros pretendíamos de traer a la cámara ese debate después del trabajo del gobierno de análisis de esas circunstancias y de la incidencia de la violencia en el deporte

análisis que podemos realizar desde el parlamento nosotros ya lo planteamos en la pregunta que hicimos

de cultura y deportes hay que profundizar mucho en ese fenómeno ese fenómeno además que gira alrededor determinados espectáculos deportivos básicamente

la violencia en el deporte tiene otras expresiones pero bueno ese fenómeno que gira alrededor de determinados espectáculos deportivos

asociaciones que giran alrededor de la práctica de esa violencia y ahora

y que forma parte todo ello de una cultura perfectamente rechazable y que parlamento tendrá que analizar y manifestar ese rechazo y las medidas o las actuaciones que probablemente se puedan

planteamos y lo analizamos desde el punto de vista del deporte y de esas noticias y de esas visualizaciones negativas por el impacto que tiene

que tienen en el deporte y que tienen en las y los deportistas

la atención en relación con lo que son referentes hoy por hoy en este tema entonces

no pretendemos todavía un debate a fondo ahora sino un debate parlamentario con documento con propuestas y con análisis exigido

sociedad ahí están los puntos de la enmienda de transacción instando a determinados colectivos y a determinados actores

tenemos que saludar que como referencia el grado de consenso alcanzado

el pasado siete de marzo desde hace un poco más de una semana cuando todos los grupos parlamentarios en el senado todos los grupos parlamentarios firmaron una declaración institucional una declaración institucional que es perfectamente clara en relación con lo que

es importante como siempre lo manifestamos y por eso esa necesidad de aislar

en el mantenimiento de la salud es un factor corrector de equilibrios de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos crea hábitos favorecedores de la inserción social y asimismo fomenta la solidaridad todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida

en la sociedad contemporánea así como un elemento fundamental para el crecimiento de nuestra sociedad

y la cultura del deporte y la actividad física siempre se ha identificado el deporte cómo símbolo de esfuerzo de competición limpia y de superación continúa

esta situación esta circunstancia este elemento este planteamiento general y desde luego que además de otras consideraciones en relación con las cuestiones legales o con las cuestiones de los convenios internacionales sobre violencia y seguridad que ahí están xenofobia en el deporte pues ahí están esos planteamientos generales tenemos un buen marco para actuar

además de lamentar profundamente la muerte del ertzaina inocencio alonso

las cuestiones que tienen que ver con el antagonismo de la sociedad y el propio concepto del deporte con las expresiones de violencia y con reforzar el control y la sanción de los

comportamientos violentos está claro y además la apelación en esa

a las instituciones públicas para reforzar marcos el marco legal seguramente existente y también el marco internacional

al máximo esta violencia ese es un marco en el que nosotros queremos debatir y ese es el marco de nuestra iniciativa y de nuestra proposición no de ley y además en ese acuerdo firmado por todos se solicitaba por parte del senado de la unión europea a través del artículo ciento sesenta y cinco del tratado de funcionamiento

de la acción de los estados miembros en materia de política deportiva promoviendo la cooperación entre los organismos responsables del deporte y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas y aficionados está claro que ahí es el marco de actuación y ahí es el marco donde nosotros queremos debatir y queremos trabajar hacerlo con el trabajo también del gobierno en relación con los planteamientos que la iniciativa que la enmienda de transacción quiera esa iniciativa fue firmada por el grupo popular grupo socialista podemos esquerra republicana los grupos nacionalistas catalanes el grupo nacionalista vasco y el grupo mixto donde se encuadran todos los demás partidos representados en el senado así que en ese sentido pues es una buena referencia

establecer aquí el marco de actuación y el marco de yo como decía con la señora

prácticamente desde la iniciativa original suya de la moción

con la señora garcía pero un poco menos esa crítica un poco descarnada que había al señor zupiria yo prefiero en este momento

otros ámbitos del gobierno más criticables y yo prefiero en este momento que el departamento de cultura y que la dirección de deportes y de actividad física se ponga

y presentarlo conforme a lo que establece la enmienda de transacción en este parlamento

y en ese sentido yo creo que vamos a preservar un poco más su capacidad de actuación en relación con el marco deportivo del que estamos hablando

ese documento será un documento para hablar del deporte y de la violencia en el deporte

y el documento no me cabe duda de que hablará del papel del gobierno por supuesto pero hablará de los clubes del papel de las federaciones del papel del propio gobierno vuelvo a decir de la dirección de deportes del papel de los ayuntamientos del papel sin duda de kirolalde al que usted se ha referido efectivamente sea un ámbito en el que se pueda trabajar y que tenga mucho que hacer pero bueno vamos a ver si independientemente de que puedan darse o no actividades y actuaciones

si en ese documento y ese debate parlamentario que podamos hacer

esos comités que giran alrededor de las políticas deportivas

hacer un análisis que puede ser crítico que puede ser constructivo en relación con kirolalde entiendo que hemos avanzado

a parte de rechazar por esta cámara pues todo lo que tiene que ver de negativo en el deporte y en este caso la violencia

un debate parlamentario sobre el deporte que yo creo que será bienvenido muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

arrazakeria xenofobia homofobia transfobia aporofobia

bengala fuego violencia en las gradas de san mamés fuera de san mamés carreras golpes cristales rotos hubo cuchillos

la del ertzaina inocencio alonso cayendo desplomado de un infarto

en el recuerdo de estos últimos días que han dado origen a esta moción y a esta proposición no de ley sobre violencia en el deporte que relacionan desgraciadamente dos términos y dos mundos en principio antagónicos la violencia y el deporte no voy a obviar la responsabilidad directa de ese grupúsculo de personas

pero que sobre la excusa del mismo fueron a montar bronca a destrozar a pegar a insultar a amedrentar y si llegara el caso porque también lo han hecho a matar no importa nada ni nadie no tienen motivo ni tienen causa porque la violencia nunca tiene causa

y eso vale también en este caso en el deporte por tanto esa responsabilidad directa existe pero eso no excluye la responsabilidad política que nos incumbe a todas las fuerzas políticas y al conjunto de instituciones digo el conjunto de instituciones

y fuera de nuestro deporte desde el grupo socialista entendemos que los sucesos se han dado aquí y ahora pero el problema de la violencia y el deporte

solo aquí y ahora en bilbao en el gobierno vasco

beltrán de heredia porque la exigencia de responsabilidad

hasta los niveles locales y a todas las fuerzas políticas que nos hayamos presentes en la misma porque la responsabilidad yo entiendo que es de todos y porque a todos nos preocupa y contestando un poco a las intervenciones anteriores claro que será importante el trabajo de kirolalde y claro que será importante el trabajo que se haga en cultura

dentro de la educación en esos valores pero tendremos que contar con más personas con más instituciones competentes para acabar con este fenómeno que es global pero lo digo porque la violencia en el deporte no es privativa de ningún país aquí no caben las banderas ni las patrias ni del nuestro

ni del francés ni lo es del olympique del athletic del real madrid o del spartak por desgracia aprovechar como excusa los eventos deportivos

para desencadenar actos violentos o actitudes machistas

con demasiada frecuencia y en todo el mundo fin de semana sí y fin de semana también

impulsada por europa en el ochenta y cinco con el marco jurídico estatal en torno a las leyes contra la violencia racismo xenofobia intolerancia en el de deporte y también está la ley dieciocho barra mil novecientos noventa y ocho ley vasca del deporte de urgente renovación y adaptación

y en este tema también es urgente que el gobierno vasco y lo departamentos presente esa nueva ley del deporte entre otras cosas

desde el noventa y ocho hasta hoy que estamos en el dos mil dieciocho con lo cual son veinte años

en ese tiempo las formas de violencia por ejemplo por circunscribirnos

en la práctica deportiva de la manera que se han insertado y los datos están ahí y tenemos que evaluar

a dicha violencia por eso decía que no todo es kirolalde no todo es cultura y deporte no todo es el gobierno vasco

la unión europea deberá de coordinar una solución y una respuesta global para un problema que es global y cuya responsabilidad es de todos y de todas

se trata de una violencia organizada eso lo conocen todas ustedes todos ustedes

como excusa pertrechada sobre pilares de intolerancia y racismo ya sea el futbol la violencia se desencadena a través del mismo contra toda la sociedad no solo contra deportistas y aficionados porque la actividad está prevista para ser violenta

para dañar romper matar y destruir la celebración por tanto del partido de futbol es una excusa es un problema entonces vuelvo a decir aquí con una respuesta sin embargo que no solo podemos nosotros pero es que no solo se trata de bengalas de agresiones de hierros de piedras de pelotas de golpes de fuero y de furia porque alguna

no solo son los insultos al adversario en el campo se trata también de la violencia sexista en los espectáculos deportivos de los insultos a las mujeres que son despreciadas por entrar en ese coto que consideran suyo los hombres menosprecio y frivolización de la violencia machista de la exaltación en las gradas del maltratador y el menosprecio a la víctima de gritar a pleno pulmón miles y miles de aficionados en un campo

cuando se ha acusado a una persona de violencia machista del ensalzamiento por tanto de los maltratadores frente a la protección a la víctima también de racismo y xenofobia de corear también miles y miles de personas

a pleno pulmón en un espectáculo retransmitido ante millónes de espectadores y espectadoras se trata por lo tanto de fomentar al fin y al cabo además de un mundo violento un mundo homófobo discriminatorio por la orientación

y racista profundamente racista que también lo han sido siempre y eso obviamente también es violencia porque es intolerancia y eso no pasa no solo un día con ocasión de un enfrentamiento

todos los fines de semana en todas las categorías de todos los eventos por tanto yo sí coincido muchas de las intervenciones y por eso la enmienda transaccional presentada que en mi opinión también como ha dicho el señor barrio

la línea de poder ser transada con todos los grupos políticos es lo que quería incidir si es un problema de todos y de todas y que no se circunscribe aquí vamos a hacer falta todos y actuar coordinadamente todos

en el senado desde europa hasta las locales y también los clubes federaciones y entidades de competición como por ejemplo

donde hubo detenidos y lo sabía la uefa desde el último enfrentamiento que hubo en febrero

un enfrentamiento de alto riesgo tanto en bilbao

por lo tanto insisto vamos a ser no sé si generosos pero sí sobre todo responsables cuando exijamos a todas aquellas personas que puedan hacer algo en

ahí también les incumbe a los clubes obviamente que les incumbe a los clubes los clubes ya no tienen

para expulsar de sus estadios y de su afición a toda persona

no deben de admitirse más excusas ni exculpaciones ni segundas oportunidades

que practiquen la violencia ni para ningún club que lo permita por tanto insisto espero la colaboración de todos los actores

en esta materia que nos incumbe a todos porque luego está la educación en valores lo decía el consejero en su intervención

que estamos construyendo también en este país y saber también

no es solo una victoria una derrota que el deporte es mucho más que el deporte es igualdad es igualdad también

es un instrumento fundamental de un estado del bienestar que facilita la integración social y que una sociedad un país y un deporte decente como creo que queremos que sea

no puede tolerar este tipo de choques violentos cargados de intolerancia de odio y de ira ni estos ni todos los que se producen todos los fines de semana y que no

porque desgraciadamente aquella árbitro a la que insultan por ser mujer no tiene hueco

eso es lo que tenemos entre manos un problema de seguridad pública no propiamente de cultura y deporte eta segurtasun arazo horren aurrean

las tintas se cargan sobre kirolalde que en castellano lleva el nombre de comité contra la violencia en el deporte y tal vez por ese nombre se produce una confusión

la cuestión es que la confusión es fácil de aclarar

en el deporte en la cancha no en los aledaños y calles adyacentes a un estadio de fútbol

la violencia en tales aledaños y calles adyacentes es un tema de seguridad

causas y consecuencias de la violencia en el deporte con especial atención a los últimos episodios de violencia vinculada al fútbol profesional masculino como hace en el primer apartado

de fútbol sobre casos de violencia insultos gritos machistas racistas xenófobos etcétera

de esta comunidad léase la real sociedad el eibar el alavés y el athletic de bilbao

mediante las redes sociales para pegarse entre ellos y que conforman nuevamente

problema de seguridad pública en la ciudad donde va a jugarse el partido de fútbol en cuestión pero es que para rematar nos queda analizar

que se encuentra en el punto quinto de su moción señora garcía y es que tiene miga la cosa

en el que no tiene atribuciones ni responsabilidades de gestión

donde supuestamente se han dado dichos errores de gestión de nota porque

los sucesos lamentables sucesos del veintidós de febrero

deberíamos de atinar mucho más y estoy de acuerdo con algunas apreciaciones que se han hecho en común

en el enfoque de la realidad de la cuestión a partir de ahí les manifiesto toda nuestra disposición a trabajar conjuntamente en el futuro en los trabajos que

se puedan impulsar desde el departamento o desde la comisión de cultura al hilo de la transaccional

eskerrik asko señora presidenta escuchando las intervenciones de algunos portavoces

que no ven un problema en torno a las políticas de prevención con la violencia en el deporte vasco a pesar de la realidad y lo que es peor no se asumen responsabilidades

desde las instituciones públicas y desde el departamento de cultura y política lingüística

de autocomplacencia y falta de autocrítica se pone el acento en la propuesta que ustedes han presentado en la labor de los clubs federaciones y asociaciones deportivas si bien

es obligación de la administración pública liderar la lucha contra la violencia en el deporte en nuestra comunidad autónoma tomando medidas de prevención concretas y eficaces

es incomprensible cómo en la enmienda de transacción que los partidos que apoyan al gobierno y el pp

en los ocho puntos que plantean al consejo vasco contra la violencia en el deporte y yo me pregunto

contra los comportamientos y actitudes violentas en el transcurso de los espectáculos y eventos deportivos porque nosotras sí que lo tenemos claro ustedes parece ser que no se aclaran o que no tienen ningún interés en tomar medidas concretas y eficaces

un decálogo de buenas prácticas en el deporte y con la elaboración de un estudio de aquí a finales de año que acabe en un conjunto de recomendaciones se va a solventar el problema de la violencia del deporte tanto

y asumir que la solución pasa por activar y validar el comité contra la violencia en el deporte no solo para que se reúna

como herramienta de prevención y análisis desconocemos los intereses que hay detrás porque es que tampoco nos han dado explicaciones creo que lo ocurrido ayer en bilbao ratifica la necesidad de poner en marcha medidas urgentes y eficaces

tal y como proponemos en nuestra enmienda agradecemos a la señora ubera su disposición por llegar a un acuerdo y por intentar buscar un consenso en una cuestión que a día de hoy

a la ciudadanía vasca y estamos de acuerdo que la cuestión de la violencia es un problema general de la sociedad circunscrito al ámbito deportivo pero es que esto es lo que estamos hablando hoy del ámbito deportivo lamentamos la actitud del grupo popular y de su portavoz el señor barrio en el transcurso de la negociación de esta iniciativa en todo momento nos hemos mostrado dispuestas a ceder y modificar nuestras posiciones sacrificando algunos de nuestros puntos con el fin de llegar a un consenso y a un acuerdo más amplio sin embargo parece ser

sobre la actividad de kirolalde y evidenciaba la inactividad de los últimos siete años pero hoy en vez de ser coherente y reivindicar la activación del consejo vasco

usted firma con el gobierno una iniciativa que contradice lo que expusieron en el pleno de control

se menta al consejo usted hablaba de una declaración institucional firmada en el senado y nosotras entendemos que es insuficiente que lo que hay que realizar es medidas concretas y eficaces y usted mismo ha mencionado que estaba de acuerdo con la mayoría de las ideas

si estaba de acuerdo por qué no pide usted una votación por puntos si estaba de acuerdo por qué no me ha llamado usted y hemos llegado a un acuerdo

en los últimos tiempos parece que el pnv el pse y el pp ponen el automático a la hora de firmar conjuntamente

entre el gobierno vasco y el gobierno estatal sin atender a la cuestión que se debate

y el rédito electoral frente a la realidad y a las necesidades de la ciudadanía vasca

pero no me respondió ya tenía un acuerdo pactado que le convenía más a quienes dirigen sus partidos flaco favor le hacemos a la lucha por la erradicación de la violencia en el deporte y señor urrutia

en algunas ocasiones al mundo del deporte la opción mayoritaria que mira por sus propios intereses y beneficios económicos en vez de reflexionar sobre los comportamientos que se producen dentro de él

y no cuenta con el resto de grupos parlamentarios no deja de ser curioso además señora romero que el pse que fue el principal impulsor de kirolalde hoy acepte

de este gobierno ni se cite ni se ponga en valor el comité contra la violencia en el deporte hoy el gobierno

con el apoyo del pp han echado el cerrojazo sobre kirolalde euskadi hoy deja de tener un comité propio contra la violencia en el deporte hoy

y no a instrumentos propios hay que seguir trabajando como sociedad por prevenir y evitar los episodios de violencia que se producen en el ámbito deportivo hemos perdido una buena ocasión desde las instituciones por lograr un acuerdo amplio nosotras

sí gracias presidenta brevedad bueno la señora garcía puede

yo lo que he querido es asegurar que el gobierno hiciese un trabajo esa comunicación quería que debatiesemos después

y la verdad que la mejor forma de asegurarlo en una proposición no de ley o en una moción una

la verdad es que es una cuestión de búsqueda de la eficacia o de la utilidad o de la oportunidad

usted así pero yo quería ese documento ese estudio y ese análisis

en relación con la materia deportiva y con la expresión violenta en el deporte y para mí nada mejor que pactarlo con el gobierno para comprometer esa actuación

kirolalde donde ha puesto usted el acento pues ni usted tiene toda la razón ni el señor urrutia tiene toda la razón usted

tenía que haber hecho mucho más y eso está bien claro no porque si se lee el decreto de kirolalde donde regula su definición y sus funciones efectivamente una cosa ha sido la deriva que haya podido tener kirolalde en relación con ese ámbito estrictamente interno

ceñido a las instalaciones deportivas y a los recintos no pero la filosofía era muy otra leyendo la exposición de motivos del decreto que lo regula y las funciones incluso que tiene que ver con

coadyuvar con espectáculos recreativos deportivos en relación con o sea ahí podría haber hecho mucho más es decir el trabajo es el que se quiere hacer

y en buena parte también el señor urrutia lo que ha hablado es de cómo ha funcionado o cómo

eso queremos traer al debate parlamentario esos organismos o este o el que se pueda

de nuevos órganos deportivos en relación en torno al deporte y a la violencia en el deporte podamos evaluar analizar y proponer al gobierno por eso mismo yo lo que quería era identificar y quiero identificar problemas para solventarlos y para ayudarle al gobierno desde este parlamento y yo creo que redefinirse las funciones de kirolalde seguramente será una de las prioridades que tengamos que hacer pero en ese sentido

en las funciones de kirolalde porque el asunto va mucho más allá y tenemos que ser muy comprensivos en este tema de una serie de cuestiones que nos afectan por eso mismo

estoy básicamente de acuerdo con lo que usted ha propuesto yo he firmado una enmienda de transacción yo me tendré que abstener en la suya

yo compartía buena parte de los argumentos que usted ha planteado hemos firmado una enmienda de transacción que también usted se podía haber sumado

absolutamente porque los ocho puntos me parece que son de la enmienda de transacción los suscribe cualquier porque lamentar el primero sin duda alguna el segundo el rechazo a toda actitud comportamiento violento cometido con la excusa del deporte el tercero

declarar la erradicación definitiva de este tipo de conductas

el parlamento vasco seguir trabajando en la erradicación de la violencia mediante la prevención de la misma

usted le ponía nombre y apellidos a kirolalde pero eso lo décimos nosotros también en el aspecto de la prevención en la

en coordinación con el departamento de seguridad insta a los club a que establezcan en sus estatutos como

evitar que las personas violentas formen parte de sus masas sociales y de sus peñas y de sus clubs efectivamente es un elemento

ha tomado en algún momento instar a que el objeto de concienciar a la ciudadanía la escuela vasca del deporte realiza una serie de jornadas formativas o informativas pues bueno está bien es del gobierno y a raíz de ahí llegamos a la comunicación que es lo que nosotros pretendíamos en relación con

que este parlamento pueda tener yo creo que hemos hecho una enmienda de transacción a la que usted se puede sumar perfectamente

que nosotros podamos hacer para mejorar su relativa ineficiencia muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gracias señora presidenta bueno voy a referirme en primer lugar

que no la he dicho antes y me parece importante yo sí que creo que

un problema solo de seguridad efectivamente yo no creo que los ataques homófobos racistas y contra la igualdad sean una cosa y la violencia

cuestión de seguridad la seguridad forma parte de la solución

pero también está dentro del acuerdo y lo insisto esto es un problema que afecta desde la educación en valores contra la violencia

un trabajo importante y con un gran consenso por lo menos trabajando en los consensos y eso lo quería dejar

precisamente esos valores los que hemos querido dejar claros aquí no se trata solo de un tema puntual se trata de un tema que afecta efectivamente a los departamentos

y también de interior pero también a todo el gobierno vasco a los clubes a las federaciones

tienen competencias y deben coordinarse por tanto incierto y mentira que esta enmienda transaccional que presentamos

y que puede tener mil efectos pero uno de ellos no es que solo hable de los clubes pero si habla de los clubes es porque tiene que hablar de los clubes porque los clubes tienen que posicionarse y tomar medidas para echar a los violentos de

especialmente eso en un primer momento en segundo lugar qué oscuros intereses tenemos el partido nacionalista vasco y el partido socialista en apoyar esta enmienda

y yo me defenderé yo no tengo ninguno nada más que trabajar una enmienda transaccional con la voluntad de que sean reflejadas las preocupaciones de todos

socialista cuando se creó ese órgano sí sí

es que también tenemos que reformar la ley del noventa y ocho que

solo le parece importante kirolalde y no hablamos de la educación en valores

no hablamos de la educación en valores no hablamos de reformar la ley no hablamos de la unión europea de que intervenga en la coordinación frente a la violencia no hablamos de eso tampoco hablamos de eso pues a mí me parece muy importante que en la enmienda transaccional

se hable de eso entonces le estoy comentando

los que figuran ahí poner el rodillo poner el rodillo mire la portavoz que habla en este momento

exactamente porque precisamente la voluntad de llegar acuerdos y consensos

no he llegado a acuerdos en los temas que me parecen importantes como llegué con la señora arana en la eliminación

de la violencia machista en los espectáculos deportivos

no lo tendré yo no lo tendré yo el problema cuando creo perfectamente que su preocupación es sincera por eso hizo una interpelación y ha hecho una moción y que su preocupación está resuelta en esta enmienda no tan bien como usted querría no tan bien como usted querría

seguro pero está resuelta y está intentando responderse por lo tanto

a mí no me vale a mí no me vale yo no la practico

no vale decir cualquier cosa en cualquier tema porque no está permitido romper todos los consensos que puedes construir en torno a aspectos esenciales como es la política de derechos humanos de convivencia y de respeto

para decir que hay intereses ocultos de dos partidos no lo permito no lo consiento

diré que puede obstaculizar otros acuerdos que son necesarios para este país y que no lo vamos a consentir pero desde luego la política de tierra quemada

sin ningún sustento lanzando acusaciones

a mí no me gusta yo no la practico y tampoco en mis puntos la voy a permitir muchas gracias eskerrik asko romero

yo también creo que el tema de la violencia ha de tratarse de una manera mucho más integral que el tema de la seguridad no sé

pero es que la iniciativa propiamente la justificación de motivos por lo menos la del señor barrio que nos ha traído aquí

a nivel europeo eso para empezar segundo

habla usted de intereses oiga yo quiero que un día

y nos digan exactamente de qué interés nos hablan o de qué intereses nos acusan porque

socialista el grupo popular y nosotros esta transacción si no es

muy parecida a la que se ha firmado en el senado y ustedes verán por qué no han entrado en el acuerdo en cuanto a kirolalde

es un comité creado por un decreto de dos mil cuatro y es un comité que ciertamente ha quedado bastante inejecutivo debido a que la ley diecinueve barra dos mil siete de once de julio

en el deporte la vació de contenidos y de competencias por lo tanto ha quedado como un comité inejecutivo donde aspectos como la prevención

de seguridad usted decía señora garcía en su primera intervención decía tenemos

no es justamente al revés es justamente al revés en el departamento de cultura existe toda la voluntad política para erradicar esa violencia y todas otra cosa es que esa violencia la que hoy nos ha traído aquí no tiene herramientas mediante kirolalde por las razones que le he expuesto anteriormente eta bilduri gauzatxo bat besterik ez

el dos de marzo interpelaba a la consejera de seguridad en relación con lo sucedido el veintidós de febrero a propósito del partido que se jugaba

un partido ligado a un hecho trágico la muerte

el primer punto de nuestra moción era mostrar ese pesar y solidaridad de esta cámara

que como dije cuando se sustanció la interpelación no quedará en nuestro recuerdo precisamente por el resultado deportivo sino que lo hará porque como decía en el curso de esos incidentes falleció el miembro de la brigada móvil porque hubo nueve ertzainas heridos heridos también de fuera de la ertzaintza y graves altercados

al estadio y que volvieron a dar una imagen de bilbao vinculado a la violencia justo lo contrario de lo que es bilbao y de lo que queremos que bilbao sea

amable y tranquila y de la imagen que queremos dar y máxime cuando vamos a tener eventos internacionales como por ejemplo partidos de la eurocopa por ello

rechazo a los hechos violentos protagonizados por la hinchada radical del athletic y del spartak y ese era el segundo punto de nuestra moción como también debemos rechazar y condenar lo ocurrido ayer de nuevo en san mamés dos guardias de seguridad resultaron heridos uno de ellos

le deseamos nuestro grupo una pronta recuperación así como

su agresión y la agresión a un periodista de el correo cuando estaba ejerciendo su trabajo de nuevo el fútbol mezclado con violencia por ello nuestra intención con la interpelación y hoy también con la moción es poner el acento en una cuestión fundamental y es separar totalmente futbol y violencia

intentando evitar que el fútbol sea utilizado como una excusa porque no es más que eso una excusa para acciones y actitudes violentas y expulsando a quienes lo hagan también debe hacerse policialmente con medidas también preventivas

para que estos sean sofocados cuanto antes lo dije el otro día todas las instituciones todos los grupos todos los equipos debemos actuar conjuntamente debemos mostrar nuestro rechazo absoluto a que violencia y deporte a que violencia y fútbol

todas las medidas que sean posibles y necesarias porque como dije el otro día aquí esos salvajes porque es lo que son

ni de sus valores les importa bien poco no ya el fútbol les importa bien poco su equipo porque su objetivo no es animar al equipo su objetivo son

violentos los había rusos en el partido del día veintidós como los había ayer franceses en el partido del olympique pero como dije el otro día los tenemos también aquí el día del partido del spartak fueron los que empezaron los incidentes en la explanada del estadio de fútbol

fueron esos a los que le fueron decomisados porras extensibles barras metálicas puños americanos navajas

todos ellos elementos no destinados precisamente a animar a su equipo los que hemos ido a san mamés los hemos visto y los tenemos identificados todos sabemos que aquí también tenemos esos violentos y salvajes que utilizan el fútbol que utiliza al athletic y al resto de equipos vascos manchando su historia para hacer lo único que saben hacer practicar la violencia y la intolerancia de hecho los detenidos del otro día la mayoría eran radicales vascos pero no solo el otro día también con ocasión del

apoel etcétera por eso yo decía el otro día que cuando desde el partido nacionalista vasco

que cómo se podía permitir tener equipos con esas aficiones y que jueguen en sus competiciones hay que señalar que desgraciadamente en euskadi

de esas aficiones que también la tenemos y por qué no ponerle nombre nosotros lo hemos dicho la afición de herri norte que es igual de radical y violenta que esas

actúe para evitar la violencia en el fútbol pero porque no queremos que la uefa impida jugar

medidas contra los violentos en el fútbol contra ellos hay que actuar evitando que estén presentes y se puede hacer porque otros equipos lo han hecho

es más el athletic por boca de su presidente el señor urrutia señaló que los actos violentos

que si constaba que alguno de los socios había tenido comportamientos inadecuados se tomarían las medidas oportunas y asimismo señaló

encontrar la mejor de las soluciones porque la violencia que se genera en torno al fútbol es inadmisible

no podemos estar más de acuerdo con una afirmación que hizo que señalaba que los aficionados y las aficionadas tienen derecho a ir al campo sin tener que padecer insultos y enfrentamientos entre grupos de presuntos aficionados que no representan a nadie suscribimos total y absolutamente esas palabras por ello en nuestra moción y aparece también en la enmienda de transacción generalizado al resto de equipos instábamos al athletic a que en aplicación de sus estatutos incoe el expediente oportuno que conlleve la pérdida

una actitud violenta con motivo de este partido y que hagan lo propio en situaciones simulares que puedan producirse en un futuro

que el athletic y seguro que también el resto de equipos vascos quiere que la violencia desaparezca de san mamés y por eso creemos que hará que los socios que tengan comportamientos violentos no tengan cabida en el club también recogíamos

ahora recogida dentro de la enmienda de transacción que hemos firmado cuando nos referimos no solo a los socios sino también al resto de los grupos pero yo quiero hacer una referencia como hacíamos en nuestra a un grupo a un colectivo radical y violento como es herri norte porque no solamente nos referíamos en estos términos a ellos desde nuestro grupo sino que también se hacía desde otras instancias por ejemplo el sindicato de la ertzantza

pedía al athletic que de una vez por todas expulsase a los miembros de este grupo ultra la utilización la incitación y la apología de la violencia y el alejamiento de principios básicos de la convivencia

y como hemos dicho la violencia los comportamientos violentos deben de ser desligados de una vez por todas del fútbol a través

necesarios con la colaboración de otras instituciones tanto asociaciones como grupos violentos como lo constituye herri norte tienen que desaparecer del fútbol por eso también nosotros instábamos a la comisión estatal contra el deporte a elaborar una propuesta de sanción

que mostraron una actitud violenta con motivo de este partido y que haga lo propio en situaciones similares que puedan producirse en el futuro hemos extendido en esa enmienda de transacción que hemos firmado junto con el partido socialista y con el partido nacionalista vasco al resto de clubes

porque la moción traía causa de una interpelación con relación que hicimos con relación a un partido determinado pero que vemos correcto que se extienda los equipos y por último nos vamos a referir a los operativos organizados con relación a este tipo de partidos porque como decía el señor urrutia antes es verdad que muchos casos este tipo de partidos y este tipo de eventos se transforman en una cuestión de garantizar la seguridad pública cuando hace quince días interpelé a la consejera la verdad es que en relación a ese operativo del día veintidós poca respuesta

en un ejercicio magistral de la máxima de que la mejor defensa siempre es un buen ataque no contestó a ninguna de las cuestiones planteadas por este grupo

de su intervención para cargar contra los representantes de la ertzaintza y para señalar que el operativo perfectamente organizado el martes siguiente pareció pareció que esa autocomplacencia se había reconducido y en el consejo de la ertzaintza celebrado el día seis pareció dar alguna muestra de sustituir esa soberbia que yo dije aquí hizo gala por una actitud dialogante cuestión que este grupo señaló

y queremos reiterarlo hoy aquí que nos alegraba y que lo vemos como positivo pero también señalábamos cuando se produjo esa reunión nuestro escepticismo

en una manera de ganar tiempo en ese conflicto que existe dentro de la ertzaintza y concretamente

de cara al operativo del partido de ayer por cierto operativo bien distinto bien distinto

en esta cámara se faltó a la verdad cuando se dijo

había sido perfecto y que no se y que por lo tanto dando a suponer que los operativos siguientes serían de la misma manera el operativo no tuvo nada que ver

se extremo la vigilancia con la hinchada de herri norte se valló san mames para evitar el contacto

se retiraron los contenedores de vidrio que no se hizo la otra vez se desplegaron muchos más agentes que el otro día se hicieron perímetros de agentes y ello como digo permitió crear un anillo de seguridad fallo es verdad la seguridad en san mames lo que permitió

esos cacheos son realizados conjuntamente entre la seguridad del campo y la propia

al que a mejorar concretamente ese punto pero hay que reconocer porque hay que reconocerlo y nosotros no hacemos criticas

que el operativo de ayer funciono mejor y que por lo tanto lo que nosotros decíamos el otro día aquí hace quince días era cierto el operativo

mal organizado como lo estuvieron otros operativos anteriores

qué diferencia qué diferencia los correcalles que vivimos hace dos años

y van a decir que los operativos han sido organizados de la misma manera la pregunta que cabe hacerse es ahora sí por qué ayer sí organizado de esta manera y antes no la pregunta que cabe hacerse es hay que llevar las cosas al límite si únicamente cuando sea cuestionado a la consejería de seguridad desde todos los ámbitos cuando parece que se ha visto peligrar el propio puesto es lo qué ha traído consigo esa temporal

y digo temporal y espero que esa temporalidad no se confirme porque la confianza de los agentes y de los representantes de los agentes en llegar a un entendimiento duró una semana es cierto que en esa reunión del día seis estaban optimistas pero en la reunión de esta semana los dos sindicatos mayoritarios han salido decepcionados

han denunciado que la consejería ha regresado a la casilla de salida

y con gran tensión señalando asimismo que es necesario que se produzcan avances y que haya voluntad real de negociación

volverán las movilizaciones por ello creemos que es necesario que esta consejería mejore

móvil y mejore el funcionamiento de los operativos para que no se vuelvan a vivir momentos extremos y de gran tensión como los que hemos vivido y que no pueden volver a vivirse la voluntad la buena intención la buena disposición de los agentes de la ertzaintza está clara dieron un claro ejemplo de ello su profesionalidad también está clara de lo que se trata es de que a esa buena intención a esa buena disposición

por parte de la consejería que se pasen de las palabras a los hechos

organizados ante eventos especiales y ante partidos como el de ayer o como el de spartak son hechos porque son

como se asegura la seguridad que es la obligación de este gobierno por lo tanto ese es el último punto el seguir mejorando

hemos firmado una transacción al que nosotros solicitamos desde aquí

se engañan quienes creen que la seguridad ciudadana es un terreno exclusivo para la derecha quienes crean que la seguridad ciudadana es la excusa perfecta para recortar libertades y derechos y quieran plantear su desarrollo en estos términos

nos tendrán enfrente quienes planteen usar la espada de damocles de la ley mordaza

pero no podrán contar con nosotros tampoco quienes pretendan volver al uso de los medios de actuación demostrados como vulneradores de derechos como las pelotas de goma

emociones al albur de incidentes violentos para pescar votos en rio revuelto nos tendrán

de los agentes de policía y también décimos alto y claro protestar es legítimo defender los derechos de las trabajadoras es legítimo pero hay un límite infranqueable quienes están llamados a proteger

la amenaza de incumplirla ni mucho menos dejar de proteger hoy no puede haber margen para quienes quieran aprovecharse

que afecta al día a día de la ciudadanía que genera inquietud legítimamente y que necesita que se pongan encima de la mesa respuestas eficaces y la izquierda

tenemos alternativas las tenemos y las vamos a defender hoy en esta cámara

pasa por escuchar a la ciudadanía por escucharla cuando dice que la inseguridad es una cuestión que en determinadas circunstancias afecta en sus vida como es natural esa insatisfacción legítima y objetiva en muchas ocasiones una respuesta por parte de nuestras instituciones imaginemos por un momento cómo se sienten los padres y madres del millar de alumnos del colegio de la pureza en bilbao que ha cerrado por segunda vez en quince días por su cercanía al estadio de san mames

qué decir de los locales que han tenido que bajar la persiana ante el miedo a sufrir daños es fácil imaginar que no se sienten especialmente protegidos instituciones estas últimas semanas sin ir más lejos cómo se sienten esa inmensa mayoría de aficionadas al fútbol que ven cómo dentro y fuera se han sucedido incidentes no se equivoquen elkarrekin podemos

ni en el alarmismo de unos ni en la negación del problema de otros

es porque creemos que merecen una respuesta una respuesta propia del siglo veintiuno y de una sociedad que quiere estar a la cabeza de europa y eso

ni con pelotas de goma la mayoría de la sociedad vasca

la sociedad vasca se ha movilizado y manifestado una y otra vez

la sociedad vasca no quiere volver al pasado con escenas de pelotazos y carreras en las calles la sociedad vasca rechaza alto y claro la violencia por eso hay que comenzar hoy diciendo que como la propia sociedad vasca nuestro grupo y el conjunto de este parlamento rechazamos sin ningún tipo

todos los comportamientos o actitudes violentas que la violencia que se produce no tanto en el deporte sino con la excusa del deporte es inaceptable

desde todo punto de vista y no admite tampoco ningún tipo de justificación ningún tipo y hay que continuar trasladando de forma sincera nuestras condolencias

le mandamos desde aquí un fuerte abrazo para acompañarles en estos duros momentos del mismo modo que deseamos una pronta recuperación a los dos agentes de seguridad que resultaron heridos ayer y a todas aquellas personas que se vieron involucradas en los incidentes

no fueron unos hechos aislados como no lo fueron los de ayer contra el olympique de marsella

al menos en diez ocasiones sí en diez ocasiones se han producido graves incidentes con la excusa de competiciones deportivas

es inaceptable es irresponsable decir que en euskadi apenas existe un problema de violencia en el deporte

negarlo es negar la realidad es querer escurrir el bulto de la mala gestión que se está haciendo de este problema

porque estos episodios violentos no se dan en general en todos los deportes no se dan en el fútbol femenino este problema un problema grave

al fútbol profesional masculino se da en torno a los clubs de fútbol de primera división sin ignorar lo que ocurre en otras divisiones inferiores y señores del pp señora llanos esto no es un problema de bilbao ni del athletic en exclusiva

de los diez incidentes graves que se han producido en los últimos cinco años cuatro se han producido en bilbao otros tres en donostia y otros tres en gasteiz esa es la realidad tan innegable como que hay un problema grave lo es que este problema afecta por igual a los tres clubs y a los tres territorios históricos de euskadi por eso señora llanos no hay por dónde coger su moción por eso señora llanos tratar de criminalizar

el athletic no es admisible por eso señora llanos

al athletic como pretende usted pasa por poner medidas y soluciones globales que se dirigen a la sociedad en general y a los cuatro clubs masculinos de primera división en particular pero más aún señora llanos usted hoy ha venido a saldar cuentas con un grupo en concreto con herri norte

con este grupo pero hoy el problema no se circunscribe solo a ellos hay más peñas y grupos protagonizando incidentes por eso señora llanos sus soluciones cargadas de demagogia que buscan señalar cabezas de turco no sirven para resolver los problemas es más

tienen un comportamiento deportivo ejemplar no podemos señalar

al fútbol masculino cuando es una minoría la culpable y la que no representa los valores del deporte

justos por pecadores no caigamos en la generalización y hagamos propuestas en base a miedos alarmas social o al dolor legítimo de las víctimas directas hacer

es de una falta de responsabilidad absoluta cortoplacista electoralista y además resulta a todas luces ineficaz

de violencias e inseguridad que la ciudadanía quiere usted hoy ha venido aquí a ofrecer como los romanos una cabeza diciendo que eso va a resolver los problemas y no es verdad no es verdad señora llanos hoy ustedes un problema que es grave quieren resolverlo con falsas soluciones y demagogia no vamos apoyarles en su intento más aun nos van a tener enfrente

no es solo porque haya un problema grave de violencia en el deporte es porque este gobierno

la nula la inexistente labor del gobierno para prevenir y erradicar la violencia en el deporte ha puesto el caldo de cultivo

ahora lo que nos toca ahora sí es evaluar las políticas de seguridad que ha puesto encima de la mesa el gobierno y sinceramente tenemos que decirles que desde elkarrekin podemos

en esta materia es necesario cambiar el rumbo de lo que se ha venido haciendo hasta este momento pero también les décimos una cosa se lo décimos de un modo constructivo nuestra enmienda a la moción del partido popular busca precisamente ofrecer alternativas para corregir esa mala dirección del departamento de seguridad

que no se hable con su plantilla de agentes es absolutamente inaceptable que se amenace con aplicar la ley mordaza

a nadie es un despropósito que la negociación de las condiciones laborales

lleve años bloqueada y generando situaciones de inseguridad en el trabajo es indefendible

en este país en el año dos mil dieciocho el debate sobre las pelotas de goma haya vuelto a cobrar actualidad y sí

lo décimos claramente del mismo modo que lo dice amnistía internacional o el consejo de europa o el propio ararteko ahora la pregunta es por qué siguen sin estar prohibidas

siguen sin estar prohibidas las pelotas de goma y estamos en esta situación porque no han querido entrar en el fondo de la cuestión que no es otro que el de medios y medidas

y digo medidas porque hoy entre otras cuestiones está en cuestión fundamentalmente el diseño de los dispositivos

la ertzaintza los políticos están acertando con el diseño

pero como le decía desde elkarrekin podemos no vamos hacer leña del árbol caído

e independiente de esos dispositivos y sinceramente si tan seguros están ustedes de que los dispositivos que diseñan en su departamento son tan buenos qué problema hay en evaluarlos de forma objetiva qué miedo tienen a que sea alguien externo e independiente quien lo evalúe van a permitirme que les sugiera que no nos convencen que sean ustedes

no son precisamente muy amigos de la autocrítica en su departamento ayer sin ir más lejos se volvió a comprobar ayer un grupo de ultras que llegó al estadio san mamés lanzando petardos bengalas e insultos

consiguió meter dentro del campo material prohibido en este caso bengalas es verdad que hemos mejorado con respecto al dispositivo de hace dos semanas del spartak de moscú pero hay mucho que hacer y

lo constatan que nadie mal interprete estas palabras es evidente que hay cosas inevitables

no hacen falta ni armas ni grandes medios para hacer daño pero una cosa es que haya situaciones que sí son evitables y que otra es que se produzcan errores con lo que todo apunta que ocurrió ayer
pero hay más hoy es necesario abordar la reforma de la ley amaitzen joan garcía anderea de policía y de la ley acabo ya y de la ley de ordenación del sistema de seguridad pública sí toca abrir el melón y toca hacerlo

hacerlo con diálogo no pueden seguir encerrados en su torre de marfil bien por haberse sentado por fin la semana pasado con los sindicatos del cuerpo

soluciones a la propia organización de la ertzaintza en su conjunto no neguemos los problemas como hizo el gobierno en la anterior sesión de control

optemos por una vía sensata que es lo que quiere una mayoría de vascos y vascas una vía que dé pasos adelante no una que retroceda en libertades y derechos hoy hay alternativas pero hace falta algo que en este gobierno brilla por su ausencia valentía para reconocer

y atajados valentía para defender las soluciones que hacen falta
y dejar escurrir el bulto mila esker eskerrik asko garcía anderea

lo importante del debate que estamos celebrando hoy está en la enmienda transaccional está tanto

en el espíritu de esa enmienda es un pronunciamiento mayoritario de esta cámara que espero que tenga más apoyos que los firmantes en el que

la solidaridad con todo el que ha sufrido la violencia se muestra como no puede ser de otra forma un rechazo profundo a quienes

se pide que haya una colaboración de todas las partes implicadas para erradicar estos comportamientos violentos y se busca también

en lo que tiene que ser un escenario de seguridad cada vez para que esa seguridad cale entre la ciudadanía y no haya episodios como los que hemos vivido ese es el contenido

me parece bien que colaboremos los grupos políticos en la tarea de la seguridad

al debate de la seguridad sobre exposición y de confrontación porque eso también se traslada de forma negativa

y porque me parece que también reduce la importancia y el trabajo que sobre la seguridad se hace ser policía no es fácil formar parte de la seguridad no es fácil tener que prepararse para lo que no se sabe que va a ocurrir mañana es harto complejo y difícil sin embargo tenemos muchos

que se dedican a ello que son funcionarios de esta administración que son profesionales y que más allá de que tengan problemas y sus dificultades incluso sus tensiones con sus mandos y con quienes gestionan esa contraprestación laboral saben sobreponerse

actuar con seguridad y dar esa seguridad a la ciudadanía asumiendo riesgo como lo demostraron ayer y como lo vienen demostrando siempre creo que ayer hay un dato positivo y es que se puede mejorar se debe mejorar

sistema policial de seguridad perfecto tampoco

es un instrumento en continua revisión el de la seguridad permanentemente hay que

autorevisarse y saber en qué se puede mejorar

una demostración de esa situación por lo tanto yo pondría en valor fundamentalmente eso

creo que cuando empezamos ya a debates sobre estas cosas nos vamos a escenarios peligrosos donde yo incluso en los que me siento incómodo y me parecen desagradables

yo creo que el fútbol ya que es una de las cosas que estamos hablando

bello y noble deporte que se juega en colectivo que se juega aportando

que se juega de manera solidaria donde interviene la habilidad de cada uno donde interviene la inteligencia la estrategia la belleza plástica que se genera

y me parece que llamar aficionados a los violentos al fútbol me parece que es un exceso yo creo que los violentos son aficionados a la violencia y que los aficionados al fútbol somos otros que no ejercemos

a distinguir esto es cierto que hay sectores de la actividad de la sociedad en la que puede haber momentos puntuales donde se concentra la violencia pero

de criminalizar a un deporte sea el que sea cuando hay tantos millónes y millónes en el mundo de aficionados que lo ven de una forma tranquila con pasión con admiración

absolutamente ninguna tensión creo que habría que quedarse

tratarlo como deporte y a la violencia hay que tratarla como violencia los que practican la violencia también tienen padres y madres y no hacemos

profesiones no hagamos tampoco no los vinculemos al deporte

es el espacio en el que se pueden sentir más seguros por la concentración de muchos ciudadanos para delinquir para ejercer la violencia

y los derechos de las personas pero démosle exclusivamente y radicalmente la consideración

donde corresponde con la aplicación de la ley y con las medidas preventivas fuera de cualquier espacio donde puedan practicar la violencia yo creo que

merece un reconocimiento una vez más

una consideración y un elogio por el trabajo que están haciendo creo que tienen derecho también a plantear sus reivindicaciones y sus mejoras de condiciones laborales como todo el mundo pero que en absoluto se deben de mezclar con la actividad que ellos desempeñan garantizar el cumplimiento de la ley y para garantizar la seguridad a las personas creo que hay que diferenciar los planos y creo que hay que llevar cada uno de ellos con la prudencia y en el campo que corresponde y creo que la iniciativa que se ha presentado junto con la

en este parlamento permite eso permite ir delimitando cada una de las cosas me parece que obedece a una visión constructiva para tratar este asunto me parece que además es propio de los partidos políticos con responsabilidades de gobierno que tarde o temprano nos enfrentamos también a tener que funcionar con operativos y garantizar la seguridad a los ciudadanos

despojemos de confrontación de sobreexposición pública a la seguridad y dotémosle de sentido común de eficacia de unidad de respeto y de consideración

esta actividad pública y yo con eso me quedaría que creo que es lo sustancial de este debate que estamos teniendo hoy y que tiene un tono

que la de algunos precedentes muy cercanos muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

sailburuok legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi en el punto anterior del orden del día de este pleno se ha debatido de manera genérica

hecho son inmediatamente trasladables a la moción presentada por el grupo popular que ahora vamos a debatir no vamos a repetirnos únicamente poner de manifiesto dos conceptos básicos que consideramos importante

con la función de promoción de valores como el respeto la tolerancia la deportividad

valores que chocan frontalmente con los episodios violentos que lamentablemente venimos presenciando estamos ante comportamientos violentos que no tienen cabida en el deporte no es aceptable ayer por ejemplo en radio euskadi un energúmeno vamos a denominar así francés decía que las bengalas los petardos los insultos es parte del folklore del fútbol sobra en el deporte sobra en el fútbol y en segundo lugar

ligado principalmente al mundo del fútbol que hay que intentar atajarlo también

y hay que atajarla por muchas vías la violencia obliga a todas y cada una de las instituciones públicas a adoptar todas las medidas necesarias para fomentar la prevención y reforzar el control y la sanción de los comportamientos violentos pero para su erradicación definitiva también es necesario impulsar medidas desde la familia desde la escuela

desde todos los ámbitos y en este sentido es de destacar el ejemplo de colaboración conjunta entre el departamento de cultura y seguridad que remitió una carta en la que tras mostrar su preocupación por la proliferación de actos violentos

le solicita que tome cartas en el asunto para que no se mezcle el deporte y la violencia estos actos violentos que nada tienen que ver con el deporte

con la seguridad y el orden público creo que compartirán conmigo que lo último debe ser tener que recurrir al operativo policial para que la gente pueda disfrutar de un espectáculo deportivo la señora llanos con su moción pretendía particularizar el tema sobre el athletic

de la manera más propicia para culminar su objetivo quería trasladar un preocupante y grave problema general global como decía anteriormente

el pasado día veintidós de febrero sí que en aquella interpelación calificó el operativo del veintidós de febrero como nos ha dicho de nefasta organización

entonces sí que ha tenido el detalle de calificar el operativo yo pensaba

pero sí que ese estuvo mejor pues no sé cómo calificarlo hasta qué punto de valoración y también creo que hay ser sinceros y creo que usted señora llanos también lo compartirá conmigo aunque no lo diga que la valoración

de febrero tuvo un factor determinante y disuasor de esa valoración

de inocencio alonso la valoración objetiva de ese operativo no sé si hubiera sido la misma en el caso de que no se hubiera dado este desgraciado acontecimiento fallecimiento y cada partido tiene un operativo distinto ningún es igual igual que ocurre con las actuaciones que realiza la guardia civil la policía nacional en otros lugares ayer mismo en el barrio madrileño de lavapies hubo un incidente en el que se saldó con un muerto

contenedores quemados bancos arrasados etcétera por lo tanto partiendo de este punto

agradecer su in extremis predisposición a llegar a un acuerdo quizás como decía condicionado por otros hechos ajenos que

alonso garcía fallecido en acto de servicio en el contexto de los hechos violentos del pasado día veintidós de febrero en la explanada de san mames y también hemos incluido en la enmienda transaccional

dentro del campo de san mames deseándoles una pronta recuperación y también al fotógrafo agredido también hay que poner de manifiesto que

la aplicación rigurosa de la ley en segundo lugar mostrábamos nuestro más absoluto rechazo a los graves hechos violentos protagonizados por aficionados radicales

por gente radical de las dos aficiones de aquella noche del athletic y del spartak de moscú y también del olympique de marsella ayer

enmienda no sé si es un olvido intencionado o no irmoki baztertu behar dugu kirolaren aitzakiaz egondako indarkeriazko jarrera eta jokabide oro edonor eginda ere y debemos también dejar claro que estos comportamientos violentos no tienen cabida en el mundo del deporte ni

creo que todos y todas los aquí presentes deberíamos aprobarlos y ratificarlos plenamente sino creo que

en que estos dos puntos se voten de manera independiente pero destacábamos también los puntos tres y cuatro de su propuesta porque como decía usted ponía el foco exclusivamente en el athletic como le han dicho aquí

de ahí que nuestra enmienda no se centraba exclusivamente en esos hechos del día veintidós de febrero en bilbao sino que iba más allá e iba dirigida a todos los club deportivos vascos instándoles

para impedir que formen parte de su masa social personas con comportamientos violentos contrarios a los valores del deporte sean de colectivos presuntamente radicales o no y a renglón seguido al tratarse de infracciones previstas en la ley estatal diecinueve barra dos mil siete se instaba a la comisión estatal contra la violencia al racismo xenofobia

con quienes sostengan conductas violentas en los recintos deportivos especialmente garantizando la prohibición de acceso

que va en la línea en su punto quinto y que sirven no solo para las personas que ejercieron violencia el pasado veintidós de febrero sino también para la posibles situaciones futuras y no solo para prohibir el acceso a san mames

deportivo radicado en euskadi tampoco compartíamos señora llanos los puntos tres y cuarto de su moción ya que hacía una

únicamente por ser miembro del mismo es más dice literalmente que se retire la condición de socio o decía a cualquier persona que sea identificada como parte del colectivo

increíble no compartimos ese planteamiento por supuesto que sí compartimos que a las personas concretas e individualizadas que muestren una actitud violenta sean de ese colectivo o no se les aplique las sanciones que legalmente corresponda nos parecía un exceso también decirle que la comisión estatal contra la violencia en el deporte

en el que existen nueve grupos ultra de riesgo que siguen activos en el futbol español

también pedía la prohibición de exhibición de cualquier simbología identificativa de ese colectivo

el informe de la comisión estatal contra la violencia de la temporada pasada en cuanto a las causas de propuesta de sanción

se han reducido de dieciocho a seis y no se hace ninguna mención especial al citado colectivo

al departamento de seguridad del gobierno vasco a que siga trabajando con la representación

con el fin de ganar en eficacia y garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los agentes de la ertzaintza en el desarrollo de los operativos

representantes del departamento y representantes sindicales se reunió el pasado día siete de marzo y se alcanzó un acuerdo para afrontar un plan de trabajo de cara a la modernización de la brigada móvil

el pasado martes día trece y estas reuniones continuaran el próximo lunes diecinueve horren aurrean gure taldeak eskatzen du

exigimos un ejercicio de responsabilidad tanto a los representantes de los partidos políticos como a los representantes sindicales dejando al margen declaraciones totalmente irresponsables que nada favorecen

pero desde el respeto al ámbito de competencias y funciones de cada cual y que estos sean beneficiosos para las y los trabajadores pero sobre todo para el servicio de seguridad público

del modelo de bienestar social con el que nos hemos dotado decía la señora llanos que hay que pasar de las palabras a los hechos

lo que sí le preguntaría con qué hechos aporta usted a ello con palabras muchos pero con qué hechos en concreto aporta respecto a la enmienda de elkarrekin podemos

es un totum revolutum que echaba en falta la referencia también al cuerpo de miñones en su enmienda entonces como ando escaso de tiempo le voy a hacer tres preguntas con relación a la cosas planteadas por usted

además de independientes para realizar esas evaluaciones que proponen en su punto tercero

respecto a los procesos de modificación y creación de la leyes creo que

para la participación ciudadana otra pregunta sería desde la toma de posesión de la señora beltrán de heredia en diciembre de dos mil doce en estos cinco años y tres meses me puede decir cuántas pelotas de goma se han lanzado en este tiempo esa sería la siguiente

y no es una pregunta bueno también podría ser que es que el departamento de seguridad pues como usted sabrá y como usted y yo tiene la obligación de cumplir el marco legal vigente el que le pueda gustar y también el que no y en este caso la ley de seguridad ciudadana está vigente y quien incumple la ley tiene que ser responsable de sus consecuencias y ya sabe que es una ley orgánica y por tanto su modificación corresponde a las cortes generales y por tanto

el fanático es el hincha en el manicomio nunca viene solo en estado de epilepsia mira al partido pero no lo ve lo suyo es

su campo de batalla la sola existencia del hincha del otro club constituye una provocación inadmisible el hincha por contra una vez por semana

son muchos comparte la certeza de que son los mejores todos los árbitros están vendidos todos los rivales son tramposos y además son sus enemigos

el humillado se hace humillante y da miedo la omnipotencia del domingo cambia la vida obediente de la semana

el empleo sin vocación o en ningún empleo liberado por un día el fanático tiene mucho que vengar eduardo galeano hitz

biolentziak noticias como la muerte

o del aficionado del depor del fallecimiento del ertzaina del fallecimiento de iñigo cabacas seguramente nos han dejado más de una vez perplejos y resulta difícil de comprender por qué

se dan estas situaciones y se produce tanta violencia tanto dentro como fuera de los campos tanta agresividad no es entendible y por extensión no es entendible vayamos a san mamés o a algún otro campo de futbol vayamos pensando quién nos toca al lado porque podemos tener cerca un fanático de estos que describía eduardo galeano

y esta sociedad tal y como está hoy en día expresa en las gradas su enfado su frustración y la agresividad que acumula en su vida cotidiana

jolastera y en ese momento saltaron todas las alarmas saltaron todas las alarmas por lo que había sucedido y llegaron los reproches de todo tipo

y en ese momento y seguramente siguiendo unos intereses concretos y determinados y sustentados también seguramente en una alarma social que en muchos casos ha venido auspiciada por los medios de comunicación

de todo hemos tenido las redes sociales incendiadas hemos tenido declaraciones del athletic club

de los medios de comunicación señalando culpables y la proposición de ley que nos ha traído hoy aquí eta proposamen horretan lehenengo puntuari buruz

dice la señora llanos que son los desencadenantes de esa situación que se generó después y dice también que se les cogieron porras

de ver el atestado policial y si vamos al folio ciento noventa y dos y siguientes vamos a ver

delante de un bar el athletic ningún aficionado radical había allí en aquel momento y en la calle

ningún aficionado radical había allí en aquel momento dice que iniciaron los incidentes estas personas tampoco es verdad

dice expresamente quiénes estuvieron allí y a ninguno

de los que el athletic tiene legalizado no es cierto eso ninguno de ellos está allí por esa razón pero dice más cosas dice que

estaban en las inmediaciones tampoco es cierto llegaron al campo una hora más tarde porque habían solicitado autorización para una concentración para esta concentración

todos ellos no estaban cuando se produjeron los incidentes orduan zure argudioa hau aurrera eramateko

hemen daude yo si quiere señora llanos se los doy para que se los lea

en la página en el artículo diecinueve y siguientes

cómo se modifican los estatutos y en el artículo setenta y ocho se explica cuál es el régimen sancionador y se dice qué es lo que hay que hacer y sabe qué es lo que hay que hacer entre otras cosas

moción que se hace en el parlamento o de un acuerdo que se hace en el parlamento en una transacción para instar

por la puerta de delante pero no utilizando este tipo de argudios y hay una siguiente y última cuestión que tiene que ver con lo que se plantea en la proposición y se dice que hay que hablar

y de qué es lo que hay que hacer eta egia da egia da ni ados nago horrekin guztiz ados nago

ezer gauzak bideratzeko edo zuzentzeko proposamenik ez la señora llanos y ahora acabo señora presidenta nos dice que la razón o una de las razones que mueven a su proposición es que hay que hacer actuaciones de manera preventiva que debemos separar futbol de violencia que lo tenemos que hacer todos juntos que tenemos que hacerlo también con planteamientos preventivos ni una sola propuesta preventiva todas son instar a hacer cosas para sancionar ni una sola ni una ni en su moción ni en la que han acordado ni una ni una porque también el señor zorrilla nos ha dicho lo mismo

ni una igual ahora me explican e igual me hacen cambiar de opinión pero de momento nire lehenengo txandan hau esplikatu nahi izan dut eta bigarrenean sartuko naiz

señora presidenta bien voy a empezar por el final

ni en la asamblea de los socios del athletic en los que usted en un caso ha defendido a esta

que está hoy actualmente y ha actuado para que esta directiva saliese en su momento ni estamos en el juzgado

de herri norte me va a llamar a mí para que le asista seguro seguro con lo cual yo no puedo conocer con detalle el punto el momento en el que se requisaron y a quién se requisaron

en ese mundo paralelo en el que todos los demás

violencia terrorista mientras ustedes veían violencia política verdad porque la vinculación que herri norte fue quien empezó los incidentes que se les requisaron eso ha aparecido

de comunicación ya digo yo no he tenido acceso al atestado pero es lo que han dicho desde la propia consejería y que herri norte está vinculada con la izquierda abertzale más radical es clara no solamente por su defensa hoy aquí

eta askatasuna tardaron veinticuatro horas en salir

mostrar su apoyo a herri norte y a todos los demás antifascistas de ayer en bilbao

dentro de esos medios de comunicación fascistas también deben estar ya digo los sindicatos policiales sindicatos como esan que creo que poco vinculados con el partido popular están que fueron los que pidieron que herri norte que se expulsase

es más el athletic no se ha sentido atacado por nuestra moción en absoluto en absoluto

es los medios adecuados precisamente para sacar la violencia del fútbol y las actuaciones

algunas de ellas en nuestra moción y que también están recogidas en la enmienda de transacción luego no se han sentido atacados para nada yo por qué me refería al athletic porque los sucesos tuvieron lugar en un

pero esa fue la razón señora garcía usted habla de agitar emoción la verdad es que ya estamos acostumbrados podemos y demagogia van absolutamente unidos

y llamarse podemos y demagogia que sería perfectamente

a la realidad porque ustedes cuando ustedes agitan las emociones entonces están escuchando a la ciudadanía cuando son otros grupos políticos especialmente el partido popular entonces estamos creando alarmismo no estamos escuchando a la ciudadanía

estamos haciendo alarmismo y usted habla de la

y yo la verdad es que me alegro

no comparta lo que el señor iglesias ha dicho alguna vez me emociona profundamente cuando veo a un manifestante golpear a la policía me alegro

un compañero me ha dicho y lo he estado buscando expresamente y lo ha dicho así

no se alegre de que los manifestantes y los radicales le golpeen

como el señor iglesias se alegra de que golpeen a la policía y claro que la seguridad

entre todos tenemos que conseguir que los violentos salgan del futbol y para eso hay que instar a los equipos a que no los admitan como socios y a los equipos a que no les admitan si son socios y se demuestra que son violentos no los admitan en los partidos de futbol y ya me voy a referir por último señor zorrilla darle las gracias al señor

con muchas de las cuestiones que ha realizado y el reconocimiento que ha hecho de la ertzaintza y usted la verdad es que me ha sorprendido como defensor indefendible porque defender a herri norte defender a herri norte

y decir que es arriesgado señalar a herri norte usted de verdad cree que cuando a zabaleta lo asesino el frente atlético alguien alertó

o sea vamos de verdad que yo creo que

una causa perdida y yo la verdad es que no voy a insistir

me quedo con el acuerdo usted dice no me da tiempo claro que el operativo fue mejor pero es que la iniciativa

esto es una enmienda a la propia actuación de la consejería en épocas anteriores que no se ha sentado a negociar que no ha organizado bien los operativos

y los operativos y me quedo con eso me quedo con eso con lo positivo de ese acuerdo y con

de las palabras a los hechos porque yo estoy en la oposición y yo pocos hechos no soy la consejera yo lo que puedo hacer aquí es controlar al gobierno que es la función que tiene

que las hemos hecho hoy aquí y con las que afortunadamente hemos acordado hemos firmado una enmienda de transacción de la cual nos alegramos enormemente y esperemos que entre todos pongamos el granito de arena para que la violencia y el futbol
nunca más vayan unidos muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

eskerrik asko señora presidenta la ciudadanía vasca quiere seguir

y eso pasa señores del gobierno señores del pnv y del pse

necesitamos apostar pero apostar de verdad por la prevención necesitamos un modelo de seguridad participado participado por la propia ciudadanía

y de seguridad como vimos ayer y además necesitamos un modelo de seguridad ciudadana eficiente ante todo eficiente pero la seguridad ciudadana no se agota en lo policial al contrario tiene muchas otras dimensiones que deben ponerse en valor

no se logra negándose al diálogo no se logra sin evaluar no se logra con pelotas de gomas no se logra con la ley mordaza

no debe aplicar esa ley mordaza a ningún ciudadano vasco y no es cosa de nuestro grupo

esta cámara este parlamento acordó en junio de dos mil dieciséis y lo hizo con sus votos a favor que fuera así

si va este gobierno a llevar la contraria a lo votado por este parlamento y si va a desdecirse de lo que votaron en junio de dos mil dieciséis

les anticipo una cosa y se lo décimos de verdad esto no es un juego retorico lo décimos con luz y taquígrafos si optan por esa vía de valentía

para cerrar el paso a un partido popular ávido deseoso de hacer demagogia

nuestra mano está tendida tendida de verdad para resolver problemas ahora bien si ustedes optan por lo contrario si siguen instalados en la autocomplacencia en la falta de autocritica y en esa deriva que no lleva a ninguna parte nos tendrán en frente de forma constructiva sin demagogias sin agitar emociones pero señalando sus errores cuando lo hacen mal les insistimos de verdad

no está hecha por hacer si son palabras vacías créannos señor

ustedes no van a dar lecciones a elkarrekin podemos de rechazo a la violencia

estaba incluido en nuestra intervención e incluso en la anterior moción que se ha debatido luego usted se la mira y lo comprueba a lo que usted me ha preguntado el problema

es que usted no quiere que se evalúe y el problema de las pelotas de goma es que ustedes

hablan de las pelotas de goma como una medida efectiva dentro de la seguridad sobre la ley mordaza

una cosa y ahora se están desdiciendo señora llanos ustedes también deberían cambiar su nombre deberían llamarse corrupción y creo que es bastante peor la ciudadanía vasca quiere prevención

se respondan como lo hacen las sociedades más punteras de europa que nuestra policía

no ponen en riesgo la vida ni la integridad física de las personas la ciudadanía vasca quiere que los clubs de fútbol se impliquen para atajar esta situación

de más y mejores recursos y hacerlo en una clave moderna preventiva y respetuosa con los derechos humanos debemos afrontar estos problemas desde el diálogo sin demagogia sin atajos sin buscar cabezas de turco nosotras creemos

donde las personas deban ser el centro de un modelo que contribuya a una sociedad más solidaria más justa más democrática y más igualitaria que la noticia

de diferentes modalidades no lo que ocurre alrededor de diferentes eventos deportivos

bai eskerrik asko bueno señora llanos yo creo que cuando he hablado de esa generalización o extensiva que pretendía lo he dejado muy claro decía que

tienen que ser sancionados pero no entendemos esa generalización por el hecho de ser miembro yo creo que no sé si usted tiene la certeza yo no la tengo pero los incidentes que se produjeron

no tengo yo esa certeza pero podríamos asegurarnos y creo que en eso lo compartirá conmigo creo que aquí se ha dicho que no hay ninguna afinidad con ese grupo lo que si defendemos es la justicia aquí se ha dicho también y yo creo que un ejemplo lo puede entender bien su partido tiene ochocientos cargos e implicados

por eso entendería usted que hubiera una iniciativa para pedir que todos los cargos del partido popular fueran inhabilitados para ejercer esos cargos públicos pues no tiene ningún sentido esas generalizaciones extensivas en segundo lugar bueno y de hecho el comunicado que sacó herri norte

el departamento no es que hace ni muchos menos la vista gorda con este colectivo

pero que podía aportar con hechos y usted dice que no forma parte del gobierno

no forma parte del gobierno pero sí que la función de impulso puede hacer cosas para mejorar la situación

aquí bueno yo creo que usted ha puesto de manifiesto y también algunas centrales sindicales esos problemas que hay en la ertzaintza y uno de ellos yo creo que lo compartimos que es el envejecimiento de la plantilla

y el segundo puede ser la carencia de medios y más agentes que va unido con el anterior sabe usted los problemas de adjudicaciones que ha habido con los vehículos por ejemplo qué ha propuesto su partido en este respecto

bloqueando ese relevo generacional y provocando un mayor envejecimiento progresivo del cuerpo de la ertzaintza y también un pnl urgente en febrero de dos mil catorce que llevó usted además que pretendía eliminar el límite máximo de acceso

y usted quiere quitar el límite para que entren personas como decía de treinta y seis o de cuarenta y cinco por qué no iban a entrar si en ese momento tenían las actitudes correspondientes ese es un primer ejemplo y otro ejemplo también le podríamos poner respecto a los presupuestos

de las políticas públicas en los presupuestos dos mil diecisiete y dos mil dieciocho que son los de esta última legislatura en concreto en el dos mil diecisiete

al departamento de seguridad sección once ninguna ninguna ninguna aportaciones hechos ninguno

en el presupuesto del dos mil dieciocho han presentado dos enmiendas la quinientos ochenta y cuatro

y los quinientos mil euros para la renovación de vehículos de miñones de araba

pronunciado hechos pero no solo eso sino que el otro día asistimos en la comisión

al procedimiento de adquisicion de chalecos antibalas y fundas para los agentes

lo ponía poco menos que en tela de juicio su procedimiento por lo tanto como dice usted me voy a quedar con su expresión

los hechos menos palabras y más hechos hay que pasar a los hechos respecto a la señora garcía

la demagogia pues bueno yo creo que tanto en la primera como en la segunda intervención es lo que ha hecho usted hoy aquí dice que no

dice que lo que pasa es que nosotros no queremos que se evalúe yo no sé el

de los operativos pero los operativos dada la cultura de mejora continua de la ertzaintza se evalúan todos los operativos están evaluados

dígame quién tiene más conocimiento que la propia ertzaintza para evaluar con todos los colectivos y la coordinación que conlleva un operativo de esta magnitud para saber

o la policía nacional no sé dígame quién tiene esa capacidad para evaluar los operativos no me ha contestado

cero se lo digo yo cero la política no nace cuando llegan ustedes estas medidas llevan aplicándose cinco años cinco años

esta noche se ha hecho uso de ese material antidisturbios finalmente el parlamento no puede instar

la ley nos guste más o menos hay que cumplirla respecto a su mano tendida pues no sé yo creo que fue el jueves le pase

quedamos en que iba a hablar conmigo y hasta este momento no se ha dirigido usted para hablar conmigo para nada o sea la mano tendida de cara a la galería me parece muy bien pero hay que ponerla

simplemente decir no sé donde tengo el papel pero bueno decir que si es así como dice pues que

la votación por puntos para votar a favor del punto uno y dos de rechazo absoluto a la violencia en el deporte y de

fallecido y dice que no se aplican medidas concretas no sé cuáles son las suyas no sé si ha escuchado el punto anterior en el punto anterior se ha hablado mucho

en esta materia para erradicar definitivamente la violencia en el futbol y en el deporte besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna eta amaitzeko

eguerdi on señora llanos efectivamente no estamos ni en la asamblea del athletic ni en el parlamento ni en san mamés perdón ni en el juzgado un lapsus estamos en el parlamento

tenemos que decir cosas que no son para justificar lo que proponemos porque eso es lo que usted pretende usted pretende que lo que usted ha dicho es lo que pasó cuando yo le digo que eso no es así usted en vez de decirme por qué no es así me dice ah no estamos en el juzgado ni estamos en la asamblea del athletic yo le he dicho lo que conozco y pone en el atestado policial y no le he dicho que yo defienda a nadie de los detenidos no le he dicho eso le he dicho que me he preocupado de enterarme de lo que pone

y usted me viene aquí a contar otra historia vale para usted como estamos aquí podemos faltar a la verdad pues mire esto es una cosa que yo no hago no

que ustedes leen demasiado lo que dicen los medios de comunicación se fían demasiado de lo que dicen algunos medios de comunicación

sin haber mirado ninguna cosa más le voy a decir otra cosa más

en su intervención para decir que nosotros apoyamos y hacemos mire

las personas de euskal herria bildu absolutamente todos sus portavoces han hecho manifestaciones en relación con este colectivo de personas y han dicho que están fuera de la estrategia de euskal herria bildu

estamos de acuerdo con lo que dicen ni con lo que hacen yo no sé qué más necesita usted eso también ha salido en los medios de comunicación igual en el que usted lee no ha salido igual no como solo lee uno pues igual allí no ha salido no lo sé

el correo español se llamará una cosa más le voy a decir en relación con lo que dice el athletic efectivamente

no se siente atacado ya lo sé y además le voy a decir más cosas un responsable del athletic habló ayer

y sabe lo que dijo que ninguno de los detenidos en ese operativo policial era socio del athletic ninguno de los detenidos le digo

es decir no a la criminalización sin más porque sí eso es lo que planteamos nada más

ante el miedo atroz de volverse a quedar el partido popular solo se ha unido usted en esta proposición rebajando sus planteamientos de una manera

y me dice después en qué planteamientos no se ha rebajado porque los podemos analizar de uno en uno nosotros nos vamos a abstener en esta propuesta y no he pedido votar por puntos nos vamos a abstener y algunas de las cuestiones ya las he explicado antes pero hay dos que creo que son importantes la primera el parlamento vasco insta a la comisión estatal contra la violencia y el racismo a que

quién y cómo ejercitan esas acciones y para qué lo hacen y con qué talento lo hacen porque miren estas son las pancartas que saca la grada de animación qué hay aquí

no pueden pedir justicia y qué piden que el athletic gane pues estas son las sanciones que pone esa institución que ustedes quieren que siga avanzando y estas pancartas que aparecen aquí abajo ni baltasar garzón primero el ilegalizador porque aquel sí que ilegalizaba todo se atrevió nunca a ilegalizar estas

señora llanos que los tribunales españoles han dicho que esto no constituía nada y han retirado todas las sanciones

pues nosotros no estamos de acuerdo en que eso se haga así y la última cuestión tiene que ver con lo que se insta al departamento de seguridad y a los sindicatos

para atajar la violencia en el deporte y para atajar estas situaciones mecanismos

plantean la utilización de pelotas de goma y hay una normativa europea que dice que no y hay resoluciones judiciales se las voy a contar también a la señora llanos porque le gusta mucho lo de la justicia que dicen que esas pelotas de goma según cómo se lancen y a qué distancia sea son letales de necesidad

para solucionar las cosas pero además ustedes aquí no dicen nada más que se reúnan y sigan haciendo cosas nosotros no vamos a dar un cheque en blanco a lo que se vaya hacer no

en la ley que tenemos que hacer vamos a traerles el marco que luego les permita adaptarlo pero no vamos a dejarles que hagan los que quieran porque no nos parece que es la forma de prevenir ni la forma de dar seguridad horregatik

ez dago ezer inportanteagorik espainiako batasunaren gainetik en realidad españa no necesita el ciento cincuenta y cinco

y lo siguen demostrando además día a día y por mencionar algunos casos pues mire los de siempre pero está el caso egunkaria el caso gara la ilegalización de partidos el caso de altsasu

un juez por muy magistrado del supremo que sea se coloca por encima de la autoridad del presidente de un parlamento y decide que el candidato con más apoyos de la cámara

no puede someterse a la investidura porque si gana va a seguir siendo independentista un estado donde las decisiones judiciales son dadas a conocer previamente por los miembros del gobierno un estado donde el tribunal constitucional acuerda a toda prisa medidas cautelares que nadie

y a continuación olvida resolver el recurso que tenía sobre la mesa todas esas actuaciones y muchas otras

llamadas nunca desmentidas a magistrados del constitucional la lista es ciertamente

y todas esas medidas decía no han necesitado para nada del artículo ciento cincuenta y cinco todas esas medidas gravísimas medidas se han tomado sin el ciento cincuenta y cinco

es un estado de excepción españa no necesita el ciento cincuenta y cinco porque españa es el ciento cincuenta y cinco y aplicar formalmente no ha sido más que una forma de tratar de humillar a todo un pueblo al pueblo catalán de menospreciar sus instituciones en definitiva de dejarles muy claro quién tiene la sartén por el mango y así de paso que nos llegue al resto el aviso

todo ha sido todo está siendo un alarde un acto de prepotencia un castigo en realidad no hacía falta el ciento cincuenta y cinco porque repito españa es el ciento cincuenta y cinco

no es que esté ocurriendo por designio divino esto tiene responsables y se llaman partido popular partido socialista obrero español y ciudadanos

esa es la lista esa es la lista de la vergüenza de la vergüenza con la que cargan el partido popular el partido socialista y ciudadanos y con el que carga la equidistancia luego dirán que no es cosa suya que eso es cosa de los jueces ya fíjense cuál es el rigor de la justicia española que acusa

a determinados ciudadanos y ciudadanas pero que renuncia a perseguirles fuera de sus fronteras no sea que vayan a hacer el más espantoso ridículo ni a bélgica ni a dinamarca ni a suiza ni a reino unido ni a luxemburgo ni a holanda nadie

de ser peligrosos delincuentes ellas y ellos desarrollan su actividad profesional de paso al más alto nivel su actividad profesional y política con toda libertad

están en la cárcel a esos se les impide defender sus ideas

los y las catalanas tanto más peligroso será que lo haga desde bruselas desde copenhague el señor puigdemont o la señora gabriel desde suiza pero la justicia española renuncia a perseguirles porque sabe que va a hacer un

izatea en elkarrekin podemos tenemos una oposición clara al respecto fue un error su aplicación

con cualquier fin en este sentido dentro de la profunda reforma constitucional que creemos que hay que hacer

por ello hemos acordado un texto en el que hemos podido coincidir con euskal herria bildu

avala y que lógicamente vamos a votar a favor pero más allá de la amplia mayoría que va a evidenciarse en esta cámara

fundamentalmente por el partido socialista que prefiere

en una loca carrera por ver quién de ellos es más centralista y conservador la verdad es que allá ellos y allá aquellos que sin rubor pacten

hoy vamos a escuchar probablemente al señor egibar ser el más soberanista de los soberanistas pero porque es su partido también el que anda negociando

se ha publicado ya una noticia que nos reafirma

que está teniendo con el gobierno español el diario el país y sinceramente hoy en esta cámara llegaremos a un acuerdo un acuerdo en torno a un contenido muy concreto necesario pero es verdad también que el acuerdo empieza y termina con este texto volviendo a la situación en cataluña

creemos que se requieren otras soluciones soluciones inmediatas y que dependen en buena medida de ellos y de ellas mismas esas soluciones en nuestra opinión empiezan por el diálogo kataluniak hitz egitea behar du

ezin daiteke sustengatu es sostenible por la

aplicación que se les ha hecho y se les sigue haciendo a la ciudadanía catalana del artículo ciento cincuenta y cinco

algo que es extraordinariamente grave también se les ha privado de la posibilidad de tomar medidas

problemas cotidianos como el paro recortes sociales en educación y salud o incluso corrupción y esto se ha hecho de una manera premeditada que era parte de esa solución ideada por moncloa y por ferraz

la ciudadanía necesita de manera urgente que haya un govern en la generalitat

y ciertamente no es menos cierto que la ciudadanía vasca una amplia mayoría de ella hace tiempo que asiste con perplejidad y distanciamiento del enredo permanente

es difícilmente entendible y compartible que meses después de las elecciones con un artículo ciento cincuenta y cinco encima con los problemas que tiene la ciudadanía catalana sigamos con esta situación de bloqueo y sucediéndose propuestas de gobiernos en el exilio dobles gobiernos convocatorias de plenos de investidura en el parlament que se suspenden por envestidura por videoconferencias etcétera

difícilmente excusable no excusable ni tan siquiera en el ciento cincuenta y cinco sobre esta cuestión

hemos sido también muy claros en elkarrekin podemos son sencillamente un despropósito y un atentado al más elemental sentido democrático de un estado de derecho

es necesario más que nunca un diálogo sincero que siente las bases de un acuerdo que permita que la fractura social no sea creciente que permita a la ciudadanía catalana volver

y por ese motivo desde elkarrekin podemos nos reafirmamos una y otra vez en la necesidad de desescalar la situación de rebajar la tensión

un diálogo que cada día que pasa es más necesario que nunca pero más difícil de producirse que el día anterior un diálogo que en nuestra opinión tiene que sentar las bases

un mecanismo que genere el acuerdo de una amplísima y transversal mayoría porque en este tipo de situaciones ni valen las mayorías de mitad más uno ni vale negarse

la receta en nuestra opinión es sencilla diálogo diálogo y más diálogo

gracias presidenta bien en tono suave y moderado para que no se me enfade la señora

yo sinceramente pensaba ingenuamente con toda seguridad

pero han pasado cuatro meses desde que la mayoría nacionalista de este parlamento de forma tan animosa como inútil

y hoy me temo que de la misma forma animosa pero también inútil va a pedir al gobierno de madrid no sé si se refiere al gobierno de cifuentes o al gobierno del señor rajoy

cambiar la constitución por su cuenta e intervenir en las decisiones judiciales esto es lo que se va a hacer y ante ello los socialistas vamos a defender otra vez lo que en cada ocasión que bildu nos ha traído la cuestión hemos defendido y pensamos que será la única salida a este embrollo

el pacto y el consenso siguiendo los procedimientos legales existentes para resolver los problemas políticos

en españa y funciona en el resto de europa exactamente igual porque la razón de ser de la democracia es esa

siguiendo las reglas de juego que se han pactado y a pesar de lo que bildu reclama y hoy lo ha hecho otra vez no hay ninguna institución europea

que han dado hasta ahora los independentistas catalanes ni una sola hoy se va a seguir negando probablemente esa oportunidad de mandar este mensaje solidario al conjunto de los catalanes y una vez más de aquí van a salir palabras de aliento para los independentistas

no lo constituyen solo los dos millónes de ciudadanos que votaron opciones independentistas también son pueblo catalán los más de dos millónes y medio que no lo hicieron y de esos se olvidan ustedes

y los hechos posteriores como la celebración de unas elecciones plenamente democráticas por cierto en contra de lo que dice el proponente en su justificación y por cierto plenamente aceptadas

catalanas sin excepción habían terminado por desarmar los argumentos que se venían esgrimiendo

en noviembre creo que fue cuando debatimos este tema esa mayoría nacionalista había asumido también esa mayoría social incluso entre quienes les votan

es que no quieren ni de lejos algo como lo que está pasando y lo que están provocando los independentistas catalanes

eitb focus y cualquier otro sondeo que se hicieron por aquellas fechas ofrecían datos muy contundentes que apenas un cuatro por ciento de los vascos están preocupados

cada dos por tres que apenas un veinticuatro por ciento respalda cosas como las que hoy se nos traen que dos tercios rechazan las actitudes huidizas y escapistas como la del señor puigdemont anterior presidente que son las que están provocando esa

cifra similar por cierto a la de quienes rechazan de plano que en euskadi importemos esa mala idea del independentismo catalán

a quienes no les gusta la aplicación del ciento cincuenta y cinco es verdad y ahí nos pueden encontrar también a nosotros porque se acordarán ustedes que este partido el partido socialista obrero español el partido socialista de catalanes el gobierno vasco

agotó hasta el último segundo para que el señor puigdemont hiciera lo que podía hacer y no quiso que es convocar unas elecciones que hubieran impedido

del ciento cincuenta y cinco y él dijo entonces muchas cosas que luego por cierto se ha desdicho como que si ganaba las elecciones iba a venir inmediatamente a cataluña

y a nosotros es verdad que no nos gusta nada que un gobierno dilapide el autogobierno que tanto costó conquistar a sus mayores que tire por la borda todo el marco legal que había pactado y que forzara la intervención de otros poderes para garantizar que la ciudadanía siga recibiendo los servicios públicos

como compartimos con esa mayoría social que la actuación del gobierno de españa en esos años es evidentemente uno de los motivos

que aquella campaña de recogida de firmas primero aquella parálisis posterior abusando de su mayoría absoluta y rompiendo todos los puentes de diálogo

para avivar agravios y para que unos y otros jugaran con sentimientos de identidad en lugar de centrarse en los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía

no fue precisamente uno de los que se significó por hacer una política social precisamente ni mucho menos todo lo contrario los socialistas somos extraordinariamente críticos con el gobierno de rajoy pero de lo que hablamos hoy es de lo que el gobierno de cataluña y la mayoría de aquel parlamento hicieron el pasado octubre al amparo de una ficción

habían diseñado en septiembre y lo que ocurrió fue que el independentismo catalán fue el que se cargó sus instituciones de autogobierno a sabiendas de que lo hacía y es el independentismo catalán

parece incluso que lo disfruta como ya hay quien se ocupe del día a día de la gente mal que bien de pagar las nóminas de los funcionarios y de abrir la persiana de escuelas y hospitales

dirimir sus cuitas internas más pendientes de resolver problemas personales que los problemas de todos y así estamos

dos mil kilómetros de distancia de los ciudadanos a los que dice que quiere representar cuando se diseñó una salida personal para que no pase apreturas económicas y pueda seguir enviando encíclicas a través de twitter se optó por alguien que tiene sus derechos civiles

como el señor sánchez pero a quien su situación procesal le impediría atender sus obligaciones institucionales y todo esto para seguir ganando tiempo en esta locura

se puede discrepar de las decisiones que adopte un juez es cierto y que afectan a la vida política institucional pero es el independentismo el que cada semana está tomando una decisión

todas las semanas jordi sánchez tiene derecho a la presunción de inocencia pero no tiene derecho a condicionar el futuro de cataluña

su candidatura puede solventar un problema del independentismo pero desde luego no solventa la gobernabilidad de un país y resulta

ese empeño independentista por no buscar soluciones políticas y encelarse

resulta cansino que en el ejercicio de su defensa quienes están en la cárcel

y que no es su ánimo reincidir y dos meses después se quieran presentar bajo un acuerdo de gobernabilidad

está prolongando la excepcionalidad por decirlo de otra manera los independentistas forzaron en octubre a sabiendas de que lo hacían la aplicación del ciento cincuenta y cinco y ahora parecen empeñados en prorrogar el ciento cincuenta y cinco lo que quieren los catalanes es recuperar sus instituciones

las necesidades de la ciudadanía y un parlamento que legisle para eso para atender las necesidades de esa gente y no que las instituciones sigan secuestradas

de los dirigentes independentistas por eso rechazamos lo que hoy plantea bildu y la enmienda transaccional que han firmado con podemos y rechazamos los argumentos de los que parte

que no existió nunca porque no hay ley fuera de la ley el de asumir como antidemocráticas unas elecciones que tuvieran plenas garantías y con la mayor participación que ha tenido unas elecciones en cataluña no se puede sustentar una resolución política

pero es que en la parte resolutiva parece que esta cámara quiere pedir una especie de reforma de la constitución por decreto

cifuentes igual porque no salga sarpullidos a nadie por decir la palabra españa

a que elimine un artículo a pesar de que esté incluido en el estatuto y esa reclamación lo vamos hacer desde un legislativo no sería mejor que de una vez por todas

en una reforma constitucional de verdad que nos diese más garantías de ejercer el autogobierno

ya se le dice al poder judicial también lo que tiene que hacer no lo que a esta cámara le gustaría sino lo que debe hacer

que intervenga también en esas decisiones judiciales eso desde una cámara legislativa en fin pasemos este debate que no va a formar parte de los hitos del parlamentarismo vasco y que se sumará al expediente como uno más en las que no hablemos ni de lo que interesa a la ciudadanía vasca

en aquello que sí hemos demostrado que sabemos hacer aquí y seguimos haciendo en euskadi apostar por el acuerdo por la negociación entre diferentes para resolver los problemas que es

señores señora consejera señor consejero señorías

ya a estas alturas las expectativas que uno tiene puestos algunos jueves en este caso viernes son escasas pero yo ya me voy satisfecho perdónenme a esta referencia personal yo ya me voy satisfecho

de este pleno me voy satisfecho pues porque oye quizá soy muy

pero hay días que no se puede esperar muchas más cosas y ya hemos aprendido también que nunca hay experiencia suficiente en política nunca se tiene el suficiente olfato en política porque yo pensaba que ustedes iban a retirar esta proposición no de ley cuando se iban acercando

el vodevil que estamos teniendo la oportunidad de conocer de lo que están haciendo los independentistas los promotores de este despropósito entre otras cosas

la gallardía de salir a esta tribuna y volver a defender lo indefendible pero bueno

y vamos a ello la señora iriarte de toda su intervención

ha venido a decir dos cosas que creo que merecen ser refutadas en cualquier caso primero que reivindicar la independencia se ha convertido en algo muy peligroso no lo que se ha convertido peligroso lo que es peligroso en un estado democrático y de derecho

no es una excepción es incumplir la ley cuando alguien vulnera altera cuando alguien se salta la ley o vulnera el ordenamiento constitucional en todos los países democráticos no hay uno que no tenga una respuesta eficaz y contundente a quien lo haga por lo tanto defender la independencia no es un problema

por no decir primero de sentido común y en segundo lugar usted ha dicho que esto es una situación inadmisible

no hay más que asomarse un poco al derecho comparado y podemos comprobar como todos los países que conformar o que están conformados o que son estados compuestos

cuando algunos de sus miembros no respetan el ordenamiento constitucional es ya conocida la referencia al artículo treinta y siete de la ley fundamental de bonn la constitución alemana que el artículo ciento cincuenta y cinco es una copia prácticamente literal

al artículo ciento veintiséis de la italiana al artículo ciento treinta y ocho portuguesa y al artículo cuatro punto cuatro de los estados unidos etcétera etcétera etcétera es decir

del mundo occidental tienen en su propio articulado mecanismos de defensa igual que los del artículo ciento cincuenta y cinco esto no es una anomalía constitucional

hay que recordarlo porque oyendo su intervención parece que esto es una isla en el mundo del derecho comparado por cierto mecanismo del ciento cincuenta y cinco que ya fue puesto en marcha en el año mil novecientos ochenta y nueve concretamente porque hubo comunidad autónoma año mil novecientos ochenta y nueve señor pastor

una serie de incumplimientos de orden fiscal por parte de una comunidad autónoma

un requerimiento que fue contestado afirmativamente y se corrigió la situación y por lo tanto no

necesario que es el que contempla el acuerdo a través del senado para su materialización y cómo acota el ordenamiento constitucional cómo acota nuestra jurisprudencia cómo acota el alto tribunal la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco bueno pues podemos acudir a la sentencia doscientos quince barra dos mil catorce

afirma literalmente lo siguiente en relación con el artículo ciento cincuenta y cinco

como medida de último recurso del estado ante una situación de incumplimiento manifiesto y contumaz deliberado

de una determinada comunidad autónoma que no ha adoptado las medidas oportunas para corregir la desviación en la que se ha incurrido por lo tanto tenemos en el derecho comparado que vienen a confirmar la idoneidad de dotarnos de este tipo de herramientas tenemos también

que reaccionó afirmativamente al requerimiento del gobierno

los motivos por los cuales se está legitimado para actuar pues bien qué es lo que sucedió aquí y siento repetirme pero parece necesario

el tribunal constitucional desde el año dos mil catorce ha venido anulando reiterada y sistemáticamente a través de numerosos autos y sentencias

el llamado o los diversos pasos que ha ido dando el llamado proceso soberanista

continuada a las instituciones catalanas para que actuaran en el respeto al marco constitucional y estatutario

durante años y críticas hay también

durante años ha habido requerimientos que han sido contestados o haciendo caso omiso

la explicación lo que intentaba el tribunal constitucional es que las instituciones catalanas cesaran

en la negación persistente y contumaz del ordenamiento constitucional y estatutario que cesaran en definitiva

de quebrar la soberanía nacional y cómo respondieron cómo respondieron ante un requerimiento de un tribunal yo creo que cualquiera de los que estamos aquí

excuso decirles las instituciones o los gobiernos que son normales

intentando dar cumplida cuenta de lo que nos requiere un tribunal esto parece básico en un

aceptando y acatando las leyes cómo respondieron pues bueno haciendo caso omiso de todas y cada una de las resoluciones y además haciendo ostentación de ese incumplimiento

posando con cinco requerimientos del tribunal constitucional con cinco resoluciones del tribunal constitucional colgándolo en twitter como si esto fuera la ley de la selva

para bochorno de la historia democrática de este país y en concreto la historia democrática en cataluña pasará esa foto a los anales

de los requerimientos las sentencias las resoluciones

bueno sí respondieron haciendo cosas concretamente con una ley diecinueve barra dos mil diecisiete de seis de septiembre de infausto recuerdo la famosa ley del referéndum de autodeterminación y con la ley dos días después ley veinte barra dos mil diecisiete de ocho de septiembre de transitoriedad jurídica que hacía saltar por los aires

sino que además también hacía caso omiso al criterio manifestado de una manera clara y rotunda por el letrado mayor del parlament por la secretaría general de la cámara por el consejo de garantías estatutarias es decir por los propios órganos de los que se dota la autonomía catalana el propio parlament

y omitiendo por supuesto todas las garantías habidas y por haber democráticas

alterando de una manera unilateral y absolutamente discrecional

de la cámara vacía ante la ausencia del resto de formaciones políticas es decir un despropósito jurídico y político de primera magnitud y de primer orden es que esto sucedió y conviene recordarlo y entonces resulta que no solo incumplió las obligaciones constitucionales concretas sino que también afectaba al interés general de españa y hubo que reaccionar y se reaccionó de una manera sosegada concreta y directa

y estableciendo para cataluña lo que no debía de ser alterado nunca y le voy a decir una cosa para terminar señora iriarte lo que ha supuesto el artículo ciento cincuenta y cinco y se lo digo de verdad honestamente créame que lo digo honestamente lo que ha supuesto el artículo ciento cincuenta y cinco para cataluña es alivio

sosiego y calma las instituciones catalanas siguen estando plenamente vigentes lo que pasa que no están presididas y no están dirigidas por unos descerebrados que están

y la ley permanentemente permanentemente pensando porque durante años la única obsesión ha sido el procés dando de lado a los intereses de una cataluña que agonizaba en lo económico en lo social en lo sanitario y en lo educativo

que a sus dirigentes políticos les ha importado un bledo y lo único que les ha interesado han sido sus obsesiones independentistas y de aquellos lodos estos polvos y voy a terminar diciéndole una cosa también que me parece

y santi vila un señor que participó en todo este proceso

hubiéramos convocado elecciones este es el nivel político y este es el nivel de la política de estos caballeros

el que había un acuerdo y se sabía que el señor puigdemont iba a disolver la cámara

un convencimiento que no solo teníamos y una información que no solo contaba el partido popular sino señores también de este lado

de esta cámara y probablemente ustedes también lo supieran pero un movimiento

pensando en su interés particular en su interés personal y no el interés de ese país al que dice amar y que dice defender mentira todo

mentira una auténtica patraña que ha acabado en un vodevil que estamos viendo ahora

una videoconferencia los otros que se pegan erc la cup mirando de lado

y mientras tanto menos mal que el ciento cincuenta y cinco está aplicándose en cataluña porque si no no habría gobierno

más pronto que tarde es que habrá un gobierno al final un gobierno que cumplirá la ley

en cataluña pero la responsabilidad última y esto es una evidencia también política más que evidente la responsabilidad última

es de los responsables políticos catalanes que son incapaces por sus intereses personales por sus cálculos electorales y políticos

le diría que sea tenaz no contumaz que la contumacia es persistir en el error

se aplica de la mano del gobierno español y convoca elecciones pero puigdemont y también

van a respetar ustedes los resultados de las elecciones del veintiuno de diciembre era la pregunta que formulaban

que todo el mundo ha aceptado los resultados de aquellas elecciones no es verdad no es verdad porque entre otras cosas pues fíjense

ocho de marzo el último auto del instructor llanera

quiere por supuesto evitar que caiga en la reiteración delictiva cuando no hay ningún delito confirmado sobre su persona sabe lo que dice

ha revalidado su compromiso delictivo integrándose en una candidatura que proclama precisamente continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia

ha revalidado su compromiso delictivo esto qué es

hubo una junta electoral se proclamaron las candidaturas alguien va a promover alguna ilegalización o de qué estamos hablando esto ha dicho la semana pasada después añade como no tiene muchos resortes

en los que fijar su posición y tamaño despropósito es consecuencia de todo ello dice que también ha reflejado

una determinación tan obcecada que su acción delictiva nunca se detuvo ante el riesgo de que pudiera conducir a un violento estallido social con posibles e irreparables consecuencias físicas en los sujetos afectados y con relevante repercusión en la convivencia del grupo social

estos son consideraciones políticas y evidentemente

habla de esa renovación de compromiso delictivo

no lo he visto reflejado en los medios de comunicación pero está en el auto del ocho de marzo sigamos si

pero es evidente que aquí una estrategia de estado hemen estatu estrategia bat dago

beharrak sortuta del estado de necesidad de cómo actuar no ya sobre el principio democrático el principio de legalidad no no

otro principio que es el de esa necesidad esa necesidad que tiene el estado para cubrir políticamente

y con toda la dinámica por supuesto judicial judicial en línea penal evidentemente y no le importa

sacrificar en el altar mayor de las razones de estado el principio de separación de poderes hasta el propio sistema democrático que no le importa no pasa nada ante las resoluciones también

las que llegan en cascada y que van a seguir enmendando la plana al gobierno español tampoco le afecta tampoco le importa entonces si se han sacrificado en ese altar en ese altar mayor de las razones de estado

vamos a descabezar a los líderes literal vamos a aniquilar el independentismo eso se dice desde el ejecutivo y después el instructor dice que esta renueva el compromiso delictivo en este panorama qué salida tenemos

cómo se construye todo eso por supuesto con voluntad y determinación y siempre hace falta un informe siempre hace falta un informe y ahí ha venido a ver

y por supuesto la guardia civil sin guardia civil no se construye esto y eso es una estrategia de estado

y no es una conspiración no sufro de paranoia sabemos lo que está sucediendo y eso es un aviso a navegantes a catalanes y a vascos para empezar

de vascos buenos vascos malos catalanes buenos y malos depende de la época y de los líderes pero aquí lo que está sucediendo es a través de esta instrucción que no va a durar otros dieciocho meses como dicen o dos años no no va a durar a lo que es

que citaba el señor sémper o presunta desobediencia ante los requerimientos del constitucional necesariamente le tienes que asociar para ir a la rebelión le tienes que asociar el factor violencia y enfocats ese famoso informe que se puede leer de arriba abajo

estás hablando de una progresiva movilización social que dé respuesta a la reacción del estado no estás hablando de violencia estás hablando de movilización democrática pues ahí tienen la concomitancia con la violencia la encuentran ahí

ustedes también vean no sé si fue pablo camino

y se avengan a tomar en consideración no le digo a que estén de acuerdo con ello a tomar en consideración trabajos por ejemplo como los de o las ideas de david cameron

entzun ditugunak entzunda esperantza gutxi me decía usted que la independencia se puede defender

la independencia de la intimidad la formal eso sí

curiosa una serie de referencias se le ha olvidado una referencia que yo creo que

diferentes elementos que es precisamente la sentencia de la corte suprema de canadá

en la que se plantea en respuesta a tres preguntas que le hizo la cámara

no podía ejercer la secesión de manera unilateral pero que si los quebequeses

para separarse el gobierno debería de negociar y no solo eso sino que además por deber constitucional debería de negociar de buena fe que yo creo que es precisamente una de las claves que se plantean aquí cuando nosotros plantemos la necesidad del diálogo la necesidad de una solución de un conflicto por las vías políticas

basado principalmente en consideraciones jurídicas lo cual se trata y creo que

político no jurídico que puede tener en algunos casos y yo creo que con la

que vamos a votar a favor hoy queda claro que tenemos una alta disconformidad con una serie de judicializaciones que se hacen en torno de la política y por tanto discrepamos de ello que pueden tener en algún caso también consecuencias

la dimensión política que tiene este conflicto ignorar la existencia de una sociedad catalana que efectivamente es plural pero que también en un alto grado hay una gran parte de la sociedad catalana que quiere decidir de qué manera

y lo que hace es llevarnos a un debate jurídico que ignora completamente cualquier posibilidad de diálogo porque para usted no existe conflicto para usted

para usted no existe conversación al respecto de esto al igual que para el gobierno de españa que es precisamente lo que ha demostrado en los últimos años plantear dar la espalda a la existencia de un conflicto político para poder dejar de lado absolutamente

de cualquier diálogo de cualquier negociación y no solo eso sino de cualquier diálogo basado en la buena fe y en la capacidad que deberían de tener dos gobiernos

de relacionarse dialogar y solucionar un conflicto que es netamente político también por otro lado

hablaba de ese estado que sacrifica en el altar mayor la separación de poderes o la propia democracia bueno yo

está seriamente dañada en el estado español pero en un estado hay gobiernos

y en este momento usted y su partido son uno de los grandes sustentos que tiene el gobierno de españa

siendo el sustento que tiene este gobierno van ustedes a seguir

que este gobierno se mantenga en el poder y les permita no solo con la connivencia del partido socialista el seguir aplicando este tipo de medidas el seguir manteniendo en vigor artículos como el ciento cincuenta y cinco

ustedes recuerden y también los catalanes que en estas elecciones en las últimas en los partidos independentistas los que defienden la vía unilateral han obtenido el cuarenta y ocho coma cinco por ciento de los votos ciudadanos

se puede embarcar en una aventura de este tipo teniendo en contra a más de la mitad de la población

sobre las cabezas de los dirigentes que da la impresión de que están haciendo todo lo posible por ir en contra de lo que quiere una buena parte de su pueblo también le hayan votado o no le hayan votado no bueno yo no sé si entiendo o no la firma de podemos en este

la reflexión que ha hecho podemos y sus homólogos en cataluña

efectivamente se criticaba determinadas medidas del gobierno central

la aplicación del ciento cincuenta y cinco a sabiendas por parte de quien lo hizo que eso iba a llegar si hacia lo que hacían y tenía en su mano

porque en fin no es precisamente un gobierno modélico ni el ultimo el señor puigdemont y el anterior del señor mas se caracterizaron precisamente por ser de izquierdas ni por tener sensibilidad social ni por nada que les pareciera todo lo contrario

de todos los recortes sociales antes que nadie con más profundidad en cataluña

vergonzoso por parte de quien lo quiere hacer no y para reconocer la realidad para ser objetivo hay que tener una mirada amplia

los fallos que tiene uno y los que tiene otro también y aquí fallos por parte de los dos ha habido bloqueo político por parte del gobierno de españa nosotros lo reconocemos

suicida por parte determinados dirigentes independentistas y se tienen que

compartido que tiene un principio fundamental que es el respeto a la legalidad y que eso iba a estar encima de la mesa más allá de simpatías o de antipatías que podían estar

los partidos independentistas porque van radicalmente en contra del espíritu con el que se constituyó

ni en conjunto ni por separado os va a reconocer jamás aventuras unilaterales como las que se han llevado a cabo

habrá que reconocer que alguna duda planteará lo que se está diciendo por parte de algunos al menos

del independentismo parece que empieza a ver serias dudas

vale la pena o no y un partido tan importante en cataluña como esquerra republicana de cataluña está más que convencidos ustedes lo sabrán mejor que yo a día de hoy

y que hay que hacer algo distinto y hasta ahora no se atreven a decirlo pero lo acabaran diciendo claramente y han llegado a pedir un candidato distinto que no esté sujeto

ni al fuga de la justicia ni al encarcelamiento y los hay

en la obcecación del ciento cincuenta y cinco porque se autosatisfacen con el victimismo permanente como han hecho siempre por otra parte pero ahora llevando
como carga de prueba a toda la sociedad catalana detrás eskerrik asko pastor jauna

señor lehendakari no se ha perdido usted gran cosa en la primera intervención no esté angustiado

pero sí es verdad que hemos asistido

a escuchar su interpretación de un auto judicial que nos ha leído con mucho detalle no es nuevo que este parlamento no es nuevo es verdad

o sorpresa pero no deja de ser nuevo que este parlamento se meta a analizar las funciones de los jueces las sentencias judiciales siempre en función de si a uno le gustan o no es decir aquí no hay una aceptación lo digo porque ustedes muchos de ustedes están haciendo apelaciones continuas a la separación de poderes lo que pasa es que es mentira porque luego a la hora de la verdad eso se queda en una mera retórica

de si le va bien a mi parroquia o no si le va bien a lo que yo creo o no creo y esto no puede ser así

hacía referencia y analizaba de manera profusa el último auto judicial decía de manera retórica pero esto qué es escandalizado ante algunas de las manifestaciones del juez llanera luego ha venido a reconocer que efectivamente es un proceso que lleva su curso y que no

también son decididos por los partidos políticos en una innovación política por su parte verdaderamente notable eso décimos nosotros pero esto qué es

de análisis político partidista de autos y resoluciones judiciales pero ahora hablaremos de la enmienda

y además pero antes de entrar en esa proposición no de ley que ustedes van a aprobar déjenme que le recomiende una cosa señor egibar no se lie esto es mucho más sencillo

complique usted la vida haciendo interpretaciones y análisis complicados esto va de cumplir o no la ley de aceptar o no el ordenamiento jurídico las normas de las que nos hemos dotado para convivir

que no la respetan quienes deciden saltárselo de una manera

y otros que creemos que oiga con sus percepciones tenemos que cumplir la ley que nos afectan y nos obligan a todos y que además está bien que los poderes públicos y en este caso los tribunales en este caso el poder judicial actúe con independencia

exigiendo especialmente a los poderes públicos especialmente a las instituciones

nos guste o no la queramos cambiar o no pero que la cumplamos porque si no la alternativa a su no cumplimiento es lo que estamos viendo

responsabilidad única y exclusiva de los dirigentes independentistas en cataluña que hoy incluso hoy después de todo lo que ha pasado siguen con este vodevil y siguen dando una imagen lamentable de sus prioridades y de su vocación política

que en dotar a cataluña de un gobierno para resolver los problemas que tienen su ciudadanos aunque yo honestamente creo que les importan

lo que ustedes van a aprobar hoy que hay que ver lo que da de sí una proposición no de ley en esta cámara verdad porque es en esta cámara las proposiciones no de ley alteran modifican la constitución

ustedes dicen que se derogue el artículo ciento cincuenta y cinco yo no judicializo los debates mi obsesión no es esa creo que mi primera intervención señor martínez

a esta cámara a debatir sobre la aplicación o no de un artículo de la constitución por lo tanto habrá que hacer referencia a un artículo de la constitución y a su

la culpa en todo caso la tendrán de estos señores no nosotros que hemos venido a responder a lo que ellos nos han planteado hasta ahí

ustedes además de modificar la constitución oigan que estos señores lo planteen o aquellos

a esto van a aprobar ustedes esto en el punto dos

es decir no solo son políticos no solo son parlamentarios que debe resultarles todavía poca cosa sino que además también se erigen en jueces y

y esto es respeto a la separación de poderes pero en tercer lugar también se erigen como parlamento que es capaz de nombrar presidentes de otras comunidades autónomas cuando dicen

y es una petición ya casi clamorosa que de una vez por todas se forme gobierno en cataluña y que permitan que los miembros encarcelados nuevamente o que están en el extranjero es decir aquellos que huyeron

aquellos que están en el gobierno puedan ser investidos definitivamente ya

de verdad y por respeto a esta cámara acudimos a estos debates intentando aportar algún argumento e intentando debatir con ustedes pero es un despropósito de lo que estamos debatiendo hoy aquí es un despropósito miren

eso es aceptar el estado democrático de derecho y la separación de poderes lo demás pantomimas y filfas lo demás pantomimas y filfas termino ya

de los dirigentes independentistas en cataluña los servicios públicos en cataluña funcionan afortunadamente afortunadamente se ha parado la fuga de empresas que quizás a ustedes no les importen ya sé que a ustedes no les importa porque todo lo que sea empobrecimiento le va mejor pero oiga

sociedades y empresas en cataluña afortunadamente se ha parado

afortunadamente cataluña ya no es noticia por la utilización torticera y fraudulenta de sus instituciones

por los independentistas es verdad que todavía es noticia por el espectáculo lamentable que están dando los partidos y los políticos independentistas pero también eso acabará muchas gracias

le he leído me llama la atención y me preocupa cuando estamos hablando de unas elecciones celebradas y estamos hablando de un acto

que ha reiterado su compromiso delictivo por participar en la lista de

léalo léalo he leído todo también la concomitancia con la violencia he leído todo el problema que tiene el partido popular y el resto de formaciones que han apoyado el ciento cincuenta y cinco es que en la previsión de ese ciento cincuenta y cinco iba a traer también otro escenario electoral

las elecciones en cuanto a listas ganó ciudadanos pero el cómputo de votos soberanistas es con diferencia mayoría absoluta

pero claro puigdemont a esos efectos o

o turull o la persona que al final no sé pueda ser el candidato

son el exponente del fracaso del ciento cincuenta y cinco por eso no pueden permitir y hay que denigrar hay que hacer

que le diga tú valiente huido lo está diciendo el carcelero y tienes al mismo juez que dice no le voy a detener porque es lo que quiere

esta es la justicia de la que me está hablando usted no pueden admitir por qué es el exponente de ese fracaso

otras dos porque claro se ha referido mucho en los medios de comunicación a que yoldi juan carlos yoldi participó en el debate de investidura

el año ochenta y siete después el año ochenta y ocho salió

que ahora será de aplicación al tiempo en cataluña pero aquí también ha participado gente que ha venido directamente de la cárcel a un debate de investidura también

elegido lehendakari ardanza era el único candidato pero elosua

participó en ese debate y en navarra también guillermo arbeloa y el propio adolfo araiz

pero en cataluña se niega por qué mire lo que viene a decir también el propio auto

la que incorpora el juez en el auto de la semana pasada dice con respecto a la restricción de la capacidad de representación

que aquí se impone dice que afecta a un candidato en quien al iniciarse el proceso electoral ya concurría la privación de libertad que condiciona hoy su representación

al momento de iniciarse los comicios no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama

tercero la candidatura presenta otros integrantes todos ellos con el mismo número de apoyos en los electores en los que no se aprecian los riesgos colectivos que tratan de conjurarse o sea que hay

tienes que dar con el candidato que guste que guste al juez o que pase el cedazo pero es que hete ahí que cuando se refiere

que lo referencia dice al invocar

el escrito del encausado elude exponer los elementos significativos que desde las premisas constitucionales expuestas condicionan el sentido de la decisión dice pese a la similitud de los casos

era los de pertenencia a banda armada y depósito de armas se trataba por tanto

con ocasión de otros permisos que ha interesado anteriormente el señor sánchez de delitos cuya comisión no se favorece en el debate parlamentario para el que se otorgó el permiso yoldi aquí podría haber hecho

pero mete esa consideración es más dice se trata de comportamientos delictivos

en la eventualidad de que el permiso condujera a un mayoritario apoyo parlamentario de su candidatura esto es

se la aceptó según su consideración venir a esta cámara

ahora como jordi sánchez puede ir a la cámara y puede tener mayoría absoluta pues no le dejo

esto es justicia a la carta esa es la realidad y lo único que pedimos en la transacción primero desactivar derogar el ciento cincuenta y cinco y todo lo que significa que repito hay una

el cierre los límites que el estado ha puesto no solamente para cataluña sino para el resto de comunidades autónomas o nacionalidades históricas dos liberar

además electa la mayoría de ellos aunque algunos han renunciado a sus cargos

no pueden permanecer más tiempo en prisión algunos han permanecido más ya en prisión

del gal y no cito que tenían condenas de diez años

pudieron estar tres meses y esos ya llevan más tiempo y no estoy haciendo comparaciones y en tercer lugar

lógica ordenada normalizada que es lo que necesita cataluña eskerrik asko egibar jauna

traemos ahora una iniciativa desde nuestra coalición una proposición no de ley que pretende aportar un grano de arena a la causa de la verdad y la memoria y esperamos también que a la de la justicia y reparación de las víctimas de la dictadura en general y de manera particular a la de las víctimas de los actos terroristas

el tres de marzo de mil novecientos setenta y seis precisamente en la ciudad

los llamados sucesos del tres de marzo supusieron unos actos de represión terrorista por parte de las autoridades franquistas

de casos aislados porque fueron parte del modus operandi de un régimen de terror impuesto durante cuarenta largos y oscuros años de dictadura pero que sin embargo tienen para nosotras y nosotros una dimensión especial por la brutalidad ejercida por la policía contra la clase trabajadora de una ciudad vasca que reclamaba una serie de derechos y mejoras laborales poniendo en evidencia el carácter no solo

si no también evidenciaba el carácter clasista de la dictadura una ciudad cuyas trabajadoras y trabajadores estaban defendiendo todos a una

a través del ejercicio de derechos que deben ser considerados fundamentales pero que no lo eran sin embargo bajo aquel régimen como son el derecho de huelga el derecho de manifestación de reunión de libre opinión política etcétera al igual que ocurre con tantas otras víctimas de la dictadura

décadas después de la masacre se siguen sin cumplir los principios de verdad memoria justicia reparación y garantías de no repetición

y no podrá haber justicia mientras no logremos construir esa memoria en base a la verdad y sin justicia no habrá tampoco una reparación completa de las víctimas

de los asesinatos y reprimidos aquel tres de marzo las garantías de no repetición se apoyan precisamente en estas patas necesarias verdad memoria justicia y reparación que hoy en día no existen para los hechos y las víctimas del tres de marzo en gasteiz nuestra iniciativa persigue eliminar algunas barreras para que se pueda conocer toda la documentación

sobre los hechos de la virulenta represión de aquella jornada evitando que bajo la argumentación o excusa

no se pueda conocer documentación relevante que pueda existir para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de aquella injusticia

esta iniciativa propone que instemos al gobierno central a desclasificar toda la documentación información datos asuntos etcétera

y que estén en estos momentos bajo la clasificación de secreto o de reservado contempladas en la ley de secretos oficiales se trata de una reclamación sencilla y en nuestra opinión oportuna que es compartida por la inmensa mayoría de esta cámara los grupos parlamentarios nacionalistas vascos

ya nos trasladaron hace un tiempo que estaban de acuerdo con la misma y que la respaldarían además finalmente viene acompañada de una enmienda de adición planteada por el grupo de eh bildu que compartimos y respaldamos también desde equo desde ezker anitza izquierda unida y desde podemos

de euskadi una adición a nuestra iniciativa que pone en valor por parte de este parlamento el trabajo el esfuerzo y la dedicación de las asociaciones memorialistas para la consecución de la justicia

y que da el respaldo a las iniciativas que desde la sociedad civil organizada se vienen dando para conseguir el reconocimiento y la reparación que merecen las víctimas del tres de marzo

la vía de la justicia es una vía necesaria y que acabará irrevisablemente en el tribunal europeo de derechos humanos

tribunales no están respondiendo como debieran ante los crímenes cometidos por la dictadura franquista una vía la de la justicia para esta cuestión concreta del tres de marzo

no son pocas más bien son muchas las dificultades que se encuentran quienes trabajan para esclarecer responsabilidades y aclarar hechos como los del tres de marzo

es el estado quien debería realizar esta labor sin menoscabo del trabajo que hagan familiares y asociaciones memorialistas como es por ejemplo la del tres de marzo pero la realidad es que el estado nunca ha cumplido con sus obligaciones al respecto

con sus obligaciones así se desprende claramente del informe elaborado a petición de esta cámara por el instituto valentín de foronda de nuestra universidad pública donde además podemos comprobar las enormes dificultades que se encuentran a la hora de realizar determinadas investigaciones

lo que pretendemos es al menos eliminar una traba de las muchas que se encuentran quienes están haciendo lo que el estado ha renunciado a hacer que hace mucho tiempo debería haber hecho y que algún día tendrá que hacer desclasificar toda la documentación que pudiera existir relacionada con el tres de marzo en gasteiz

estableciendo claramente las responsabilidades políticas y penales que puedan derivarse la ley de secretos oficiales otorga de manera exclusiva al consejo de ministros y a la junta de jefes de estado mayor la potestad de calificar con la categoría de secreto o de reservado la documentación e información

o poner en riesgo la seguridad y defensa del estado la cancelación de dichas calificaciones corresponde en virtud de esa misma ley

el gobierno por lo tanto mediante acuerdo de consejo de ministros puede perfectamente en estos momentos desclasificar toda aquella información que tenga relación con los sucesos de gasteiz que haya sido clasificada por cualquiera de los consejos de ministros existentes

y eso es sencillamente lo que se propone con esta iniciativa no hay razones entendemos para no hacerlo oponerse a una iniciativa como esta

con estos hechos para evitar que se aclaren o demuestren ciertas responsabilidades cuarenta y dos años después de aquellos hechos

en peligro la seguridad y la defensa del estado que son los únicos supuestos recogidos en la ley para poder mantener como clasificada la información

cómo podría considerarse que pone en peligro la seguridad del estado conocer información relativa a las luchas democráticas y la represión contra las mismas ejercida por la dictadura hace cuatro décadas lo único que esto puede poner en peligro

impunidad con todo lo sucedido durante las cuatro décadas de dictadura

años de la misma durante los últimos años de la dictadura franquista la contestación social de la misma por parte de la clase trabajadora y las clases populares fue una constante

reivindicando los más elementales derechos democráticos derechos laborales derechos sociales

y los conflictos obreros eran una de las principales puntas de lanza de aquella lucha democrática contra un régimen ilegítimo impuesto por la fuerza de las armas y la traición a través de métodos bárbaros violadores de los más elementales derechos humanos y principios democráticos mientras las élites del país

el cambio de chaqueta para convertirse en los nuevos demócratas de toda la vida en los barrios y fábricas de todo el país

socioeconómicas del régimen en sus propias carnes vencían el miedo a la represión para salir a defender sus derechos y en última instancia a acabar con la dictadura

en aquel año de mil novecientos setenta y seis con numerosos conflictos laborales en multitud de empresas algunas de las reivindicaciones de aquellas luchas

de cuarenta horas o el cien por ciento de salario en caso de accidente o enfermedad yo no puedo seguir sin pararme a reflexionar

reivindicaciones tienen que seguir siendo peleadas hoy en día cuarenta años después incluidas entre aquellas reivindicaciones también

pues como se constata en las reivindicaciones expresadas en gasteiz aquel año las trabajadoras reclamaban contra la injusticia de que los hombres cobrasen

trabajos todas esas luchas puestas en común

bajo un régimen donde el derecho fundamental a la huelga no existía y era perseguido con severidad el tres de marzo de aquel año se había convocado un paro total en la ciudad un paro que fue secundado masivamente consiguiendo las y los trabajadores parar la mayoría de empresas incluidas las que no tenía en esos momentos conflictos abiertos

un apoyo que también fue practicado por estudiantes por el comercio amas de casa etcétera pero el régimen no estaba dispuesto a tolerar tal grado de subversión

reivindicando derechos democráticos y sociales la policía actuó con dureza desde la mañana utilizando fuego real ante cualquier intento de protesta o manifestación la policía armada se cobró sus primeras víctimas desde la mañana hiriendo de

pero fue por la tarde cuando se desencadenaron los más terribles acontecimientos cuando la policía

allí se realizaba la asamblea general informativa de la convocatoria de huelga como ustedes saben de sobra no voy a detallar por eso los hechos que ustedes ya conocen y que se sucedieron cuando la policía comenzó la operación de desalojo represivo de aquella asamblea que acabó con cinco asesinados

hoy día sigue sin hacerse justicia por aquellos hechos y no se han dirimido las responsabilidades penales hace dieciocho años que este parlamento a iniciativa de izquierda unida

impunes y sin clarificar siguen hoy en día lamentablemente hace más de diez años que el instituto valentín de foronda explicitó en su informe

bajo las órdenes de alguna instancia de la cadena de mando cuyo extremo último era el gobierno hace tiempo que sabemos que existen responsabilidades penales

romualdo barroso chaparro josé castillo y bienvenido pereda pero estos no han tenido el debido reflejo en los tribunales hace tiempo que este parlamento consideró responsable político a aquel gobierno de arias navarro son responsables políticos el que entonces era ministro de la gobernación don manuel fraga iribarne

rodolfo martín villa y el entonces ministro de la presidencia alfonso osorio y en mi opinión también

pero una cosa son las responsabilidades políticas y otras las penales no sabemos en qué punto de la cadena de mando recae la mayor responsabilidad de aquellos hechos pero sí sabemos que la impunidad continua hoy en día y que lo hecho hasta ahora por las instituciones no es suficiente

hoy pretendemos aportar con esta iniciativa otro pequeño paso que pueda ayudar a conseguir los objetivos ineludibles de verdad memoria justicia y reparación y garantías de no repetición

creemos desde nuestra coalición que debemos hacer todos lo que esté en nuestra manos para garantizar estos principios sobre unos hechos que fueron considerados por aquel policía armada

el objetivo de esta proposición no de ley es hacer esa modesta aportación consistente en presionar al gobierno central a desclasificar cualquier documentación o información que pueda ayudar en la causa de la verdad la memoria la justicia

del aparato franquista aquel tres de marzo de mil novecientos setenta y seis yo tengo que agradecer la posición de la mayoría de los grupos de esta cámara

y sobre todo tengo que agradecer y creo que tenemos que agradecer la labor que fuera de estas paredes

muchas asociaciones y colectivos de memoria histórica porque algún día tendrá que haber verdad memoria justicia
y reparación de verdad eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

gracias al señor hernández por traer de nuevo

debatido muchas veces en este parlamento sobre la que nos hemos pronunciado muchas veces y tiene un matiz distinto en relación con la petición pero bueno

ha expuesto y por recordarnos una vez más cuestión que ya habíamos hecho en múltiples ocasiones en este parlamento a través de iniciativas parlamentarias pero también a través de comparecencias de informes recibidos incluso de una comisión especial que trabajó hace unos años pues en los sucesos del tres de marzo y sus lamentables consecuencias

manifestar nuestra condena por los sucesos lamentables de aquella época la valoración de una actuación policial desproporcionada y brutal y nuestro recuerdo desde luego como siempre lo hacemos a las víctimas

desde luego políticas que luego tuvieron el devenir que tuvieron y que tuvieron también las consecuencias que tuvieron

últimamente nos suele presentar algunas iniciativas que sobrepasan las posibilidades de este parlamento y más a través de proposiciones no de ley efectivamente habla de decisiones que hay que tomar o que tienen que tomar otros en este caso el gobierno decisiones complicadas seguramente a veces difíciles pues de entender o de asumir

decisiones políticas de poderes públicos en aplicación de leyes vigentes y

y en el ordenamiento jurídico y son ejercidas por quienes tienen que hacerlo

en ese sentido se toman en base a decisiones y criterios legales que no han sido reformados y ese es el elemento fundamental

poníamos el acento en la posibilidad de que este tema de la desclasificación de estos documentos a los que usted se refiere pero de muchos más puede estar dentro de un debate de reforma de la ley de secretos oficiales o de una nueva ley de documentos oficiales y de las fórmulas de su desclasificación

ese es el marco de la reforma el congreso de los diputados e incluso

instar al gobierno en el propio congreso de los diputados

que quiere que hagamos aquí es decir supongo que algún compañero suyo ya lo

conseguirá con más proximidad no le digo con la eficacia de pedir a alguien

décimo mayoría parlamentaria pero en cualquier caso podrá hacerlo en el congreso de los diputados yo digo en una vía declarativa como es una moción una proposición no de ley o una vía legal como es la reforma de la ley de secretos oficiales o una ley que ya sabemos que está en marcha que está en trámite y que que dé frutos así que en ese sentido nosotros entendemos que ahí debe estar un debate de estas características que a nosotros

lo que usted pide puedo desearlo y me puede interesar como ciudadano como persona

y como interesado en ese asunto pero mi capacidad ha sido sobrepasada

de desclasificación y que chocan o que topan con la aplicación de la ley o con quien tiene que aplicarla y la interpretación que hace de la misma en relación con la seguridad del estado en relación con documentos donde se fundamenta el secreto de las documentaciones que también a mí

para superarlo como le decía antes nos parecerá bien que se desclasifiquen este tipo de documentos y seguramente muchos otros

y desde mi punto de vista y en el de mi grupo en el marco del respeto a las decisiones de los gobiernos este

que podían haber hecho cuestiones similares en relación con determinados documentos y

a las decisiones de los gobiernos y aquí además no estando dentro del asunto declarativo de lo que es una proposición no de ley no es la primera pidiendo estas cuestiones y bueno y dan de sí lo que dan de sí entiendo que en el congreso de los diputados usted tendrá un mayor terreno de juego seguramente usted o su grupo no y además

en la petición de estas cuestiones de la desclasificación de documentos pues bueno en las vías

ante los tribunales no es la primera vez que eso pasa

los interesados han podido acudir a tribunales en marcos de referencia y de actuación pública y los tribunales incluso han dado la razón es decir yo

en la investigación de los gal que los tribunales dieron la razón a quienes exigían

los procedimientos también existen no la justicia

usted también completa su iniciativa con una enmienda de transacción o de enmienda de adición que habla de la justicia

de buscar la satisfacción en la justicia de sus pretensiones la justicia española la justicia internacional los tribunales de derechos humanos ahí están las medidas y desde luego las decisiones de los tribunales

me gustaría que se desclasificaran documentos de esas características seguro que sí pero yo no tengo que tomar ninguna decisión en ese sentido

no forma parte de mis responsabilidades ni tengo todas las claves además en relación porqué no se desclasifican o porqué se desclasifican y entiendo

y tengo que hacerlo aquí y tengo que defender los criterios y las actuaciones del gobierno en esta serie de cuestiones yo no quiero usted dice el que no vote a favor de esta proposición no de ley es que quiera que se oculte no no yo no quiero que se oculte nada yo no quiero que se oculta más el que no quiera el que no vota a favor

en este tema o en cualquier otro o sea en ese sentido no vea que yo quiero ocultar nada

hacer aquí y lo que hago aquí como representante del grupo popular es entender que son las decisiones del gobierno en aplicación de leyes vigentes muchas gracias

bai eskerrik asko lehendakari andrea a las diecisiete diez del tres de marzo de mil novecientos setenta y seis policías armados de la compañía de reserva de miranda de ebro y de vitoria entraron en la iglesia san francisco en el barrio de zaramaga usando gases lacrimógenos para desalojar

aquellos trabajadores y a pocos metros de la puerta les esperaban policías armados apuntándoles con pelotas de goma y en un momento dado disparando armas de fuego en el mismo lugar de los hechos fallecieron tres de aquellos trabajadores pedro martínez francisco aznar y romualdo barroso gravemente heridos morirían poco después josé castillo

fue la mayor matanza de la transición y nunca fue aclarada porque ni se investigó ni se celebró un juicio egia justizia eta erreparazioa

saltando la autorización eclesial obligatoria por el concordato vigente cuando decía el señor semper que había que obedecer la ley pues no se obedeció sabemos que el capitán de policía

lo que dijo para justificar aquella masacre dijo se utilizaron hasta agostarse todos los métodos antidisturbios y tras su carencia fue precisa la utilización de armas de fuego

sabemos que mintió también cuando habló del empleo de armas de fuego por parte de trabajadores

lo sabemos por las grabaciones hechas por radioaficionados dijeron hemos contribuido a la paliza más grande de la historia esto ha sido una masacre verdad egia es también oír en esas grabaciones el intercambio entre diferentes policías qué tal está el asunto ahora por ahí cambio

ya me contarás como está la calle cambio y la respuesta es muchas gracias buen servicio

la verdad que sabemos las pruebas las grabaciones sonoras los testimonios nunca nunca

y esa es hoy la cuestión porque el derecho a la verdad está íntimamente ligado con el acceso a la información porque el conocimiento supone una garantía de transparencia y

porque se somete a la ley del sesenta y ocho sobre secretos oficiales que es la que prevalece del sesenta y ocho señor barrio demócrata la del sesenta y ocho si es la reforma del sesenta y ocho demócrata la del sesenta y ocho curiosas palabras

esta ley impide la revelación de documentos cuyo contenido ponga en peligro la seguridad y la defensa del estado bien esa es la pregunta los archivos que tiene el estado sobre la masacre del tres de marzo ponen en peligro la seguridad o la integridad del estado no la respuesta es que no

no buscan preservar al estado sino a autoridades y funcionarios

relacionadas con la causa que puedan tener una responsabilidad penal

entonces ministro de relaciones sindicales y fraga iribarne entonces ministro de gobernación

y otros nombres también de aquí de vitoria gasteiz compañeros también de correrías de los responsables de aquella masacre esos que fueron cómplices y participes del régimen golpista franquista

muchas y cuál es el resultado de todas ellas ninguno ninguno señor barrio porque vaya papelón que le ha tocado a usted hacer hoy aquí venir aquí vamos le han debido

absolutamente inexplicable eso también es egia batzuk

del ochenta y nueve cuando hubo noventa y seis muertos aficionados del liverpool

sino porque su lucha por conocer la verdad de lo que pasó la lograron cuando en dos mil doce

que la policía fue la culpable de la tragedia la policía

la policía verdad y reparación cuando también el primer ministro ofreció sus disculpas en la cámara de los comunes

porque desde entonces han seguido peleando para conocer la verdad exactamente igual que los del tres de marzo y en estos momentos tienen en la cámara de los comunes inglesa

que establece precisamente el requerimiento a fuerzas policiales y a autoridades públicas a ser transparentes y veraces en los procedimientos legales incluyendo sus propios fallos

yo creo que todos pensamos que estaremos en una sociedad más avanzada democráticamente cuando podamos aspirar a una ley así

a una ley así pero también creo que los contumaces que decía el señor sémper

democráticamente porque los poderes públicos solo tienen legitimidad

eso que no hacen tampoco con el ciento cincuenta y cinco eso es todo lo que las autoridades públicas del estado español llevan sin hacer desde el setenta y seis y la verdad tal y como proponen las familias de hillsborough tal como proponen las del tres de marzo es el requisito fundamental para acceder a la justicia

sabemos que ante la gravedad de los hechos un juzgado de vitoria en el setenta y seis instruyó el caso pero pronto tuvo que inhibirse porque al reconocerse que se habían utilizado armas de fuego el tribunal de orden público el famoso top de aquellos años

y en un momento dado la sala de competencias del supremo zanja al obligar a la justicia militar a asumir el caso en marzo del setenta y siete la justicia militar reconoció la existencia de un delito de homicidio

procedió a su sobreseimiento provisional y como sabemos quedó prescrito

todos los procedimientos abiertos en españa se han sobreseído archivado y desestimado

en el tribunal de orden público el constitucional y el supremo por prescripción

ekintza horiek ez zirela delitu y la respuesta del gobierno español tanto el actual como todos los anteriores reafirman la convicción de que son sucesores directos de aquel régimen franquista con el cual no se produjo ninguna ruptura

reconociendo los hechos la responsabilidad y pidiendo perdón siguen pervirtiendo los principios democráticos para tapar sus vergüenzas negar sus responsabilidades

a sus colaboradores a los colaboradores del régimen franquista al que sucede hoy nadie discute que los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y por tanto

vemos también el último resultado del tribunal constitucional para no admitir la demanda de amparo presentado por la asociación tres de marzo asegurando que el caso no tiene

constitucional la mayor tragedia la mayor masacre de la transición no tiene

constitucional para ese tribunal bueno desde luego nadie va a dejar aquí de seguir buscando la verdad y la justicia agotadas las vías judiciales españolas se está buscando la manera de acudir al tribunal de derechos humanos de estrasburgo y a otros estamentos internacionales también como naciones unidas pero verdad justicia y reparación también se les niega la reparación

la asociación de víctimas del tres de marzo denunciaba también hace escasos días que no se ha producido el más mínimo gesto de reconocimiento por parte del estado

además el gobierno español va a abrir en gasteiz un centro memorial que va a dejar fuera a las víctimas de aquella masacre el centro memorial víctimas del terrorismo las va a dejar nuevamente fuera la asociación cree que es el del memorial un modelo de memoria excluyente basado en la impunidad

que es el que pretende imponer este gobierno español y las asociaciones del tres de marzo han hecho un llamamiento especial a las instituciones vascas para que se desmarquen también de él se lo han hecho al ayuntamiento de vitoria y se lo han hecho al gobierno vasco que están presentes en el patronato

de que igual vulneración igual tratamiento que marca la legislación internacional

gracias señora presidenta buenos días

de nuevo a todos y a todas y en primer lugar gracias al señor hernández no sé si repetida o no y al grupo que representa por traer esta iniciativa al parlamento y por volcar de nuevo en el mismo por tanto memoria memoria histórica y memoria democrática

sobre las que la misma tengamos que pronunciarnos obviamente vamos a votar lo ha reconocido que se lo transmitimos a favor

de su propuesta y vamos a votar también a favor de la enmienda de adición presentada por el grupo eh bildu se han dicho los nombres de las personas

ellos fueron los asesinados junto a ellos cientos de heridos la mitad por lo menos de bala sí estaban haciendo

sus derechos laborales luchando frente a los topes salariales luchando también

señor hernández y estaban haciendo una huelga

franco había muerto pero el franquismo no y el estado franquista respondió con todo entró con todo y como algunas

a las pruebas que hay en el dictamen del informe realizado

estaba claro que iban a desalojar la iglesia fuese como fuese y así lo hicieron lo hicieron con violencia

que aún todavía no han tenido acceso a la verdad porque no han podido saber y esclarecer los hechos en la justicia no han podido acceder

que ellas han pedido y establecido no se habla la primera vez en este parlamento efectivamente se ha hecho hasta un dictamen después del de valentín de foronda creo que en el dos mil ocho hubo un dictamen

y en ambos se ha hecho verdad de lo sucedido que a lo mejor esa verdad no coincide con la que está en algunos de los documentos oficiales que eran informes policiales que precisamente

los asesinos las personas que asesinaron a estas víctimas no lo han olvidado tampoco otras instituciones como las juntas generales de álava o el propio ayuntamiento de vitoria que han actuado en los tribunales para reclamar el reconocimiento reparación e indemnización

que no podían más y efectivamente el tribunal constitucional entendiendo que

de álava no tenía relevancia constitucional pero también

anterior a la tipificación de estos lo archivó por qué lo archivara nosotros creemos que debemos seguir apoyando a las víctimas de seguir apoyando a la plataforma que ha mantenido la reivindicación de estas víctimas cuando la política a lo mejor miraba para otro lado y apoyarles para acudir

en algún momento a la comisión de derechos humanos de la onu para lograr esa verdad judicial también que se corresponde con la verdad histórica o la verdad política que hemos podido tratar tanto académicos como parlamentarios y parlamentarias aquí y

del país vasco a estas víctimas sí es verdad que se ha intentado hacer un reconocimiento en la vía administrativa supuso un hito el que las cubriera el decreto de víctimas

de sufrimientos injustos el que dictó idoia mendia siendo consejera de justicia también se las incluyó en la ley de memoria pero es verdad que ni con una cosa ni con otra han tenido acceso a esa verdad judicial conocemos los nombres por supuesto a pesar de que no nos lo haya dicho un tribunal los conocemos todos

ubicada en miranda jesús quintana saracibar el gobernador civil de álava en aquel momento rafael landín

y el director general de la guardia civil ángel campano

todos esos fueron los responsables de los asesinatos de esas personas y es verdad que eso no ha sido esclarecido todavía en un tribunal a mí sí me gustaría

junto con el de garantía de no repetición el de memoria el de reconocimiento y el de respeto pero también querría subrayar los intentos que desde las instituciones se han hecho de dar un contenido

de la policía y lo quiero subrayar porque en ese sentido no se les ha dejado solas

en otros momentos las instituciones o los tribunales

en que todas las víctimas tienen derecho a la verdad a la justicia y a la reparación pero todas sean víctimas de un estado franquista que actuó vamos con ira con sangre y con fuego frente a unos trabajadores y unas trabajadoras que intentaban mejorar sus derechos los hoy también y esto comprometida cuando son víctimas de abusos policiales los hoy también pues por ejemplo cuando no se trata del estado ningún funcionario del estado

todas tienen derecho a esa verdad o por lo menos a intentar esa verdad y en esa verdad nos tenemos que comprometer

yo me comprometo a hacerlo y el grupo socialista también por eso no voy a entrar en el debate de que me haya considerado o no los distintos gobiernos sucesora del

no considero una ofensa entre otras cosas porque no ofende quien

sentirme en ningún momento interpelada cuando muchos de mis compañeros estaban en los alrededores de esa iglesia aquel día no yo

pero muchos de mis compañeros y compañeras sí lo estaban y sufrieron la violencia del régimen franquista

y fuera de vitoria pero no entro en ese debate porque la réplica conllevaría ensuciar el debate sobre los derechos de las víctimas que nos ocupan ahora que son las del tres de marzo y por eso nosotros décimos sí a la desclasificación sea como sea con la reforma que ha presentado el partido nacionalista vasco de la ley sea con la proposición de ley de reforma de memoria histórica que crea la comisión de la verdad por parte del partido socialista para esclarecer todos estos

dilucidados en los tribunales pero me comprometo

hasta el momento de no insisto no ensuciar contestando a una acusación como que yo fuera sucesora del régimen franquista porque mi

ha pertenecido a esos gobiernos que ha considerado usted

y obviamente no puedo compartirlo aunque tampoco voy a responderle como se ha respondido en otras ocasiones porque si yo le respondo a usted y usted a mí como ha hecho en la primera interpelación con ese insulto precisamente

es el apoyo que usted y yo compartimos juntas a esas víctimas del tres de marzo en ambas cosas en el derecho a la verdad la justicia

y en el respeto que deben a no ser utilizadas en un conflicto político o en un debate político que solo puede perjudicarlas muchas gracias eskerrik asko romero

esan bezala el día tres de marzo de mil novecientos setenta y seis de tan triste recuerdo

han transcurrido cuarenta y dos años y durante todo este tiempo las víctimas de aquellos sucesos han reclamado de manera incesante memoria reparación y justicia son varias por otra parte las iniciativas sociales e institucionales

han intentado restañar en parte aquellas heridas la memoria sigue viva sin embargo la impunidad ha perdurado hasta nuestros días por eso vamos a apoyar la iniciativa de elkarrekin podemos y la enmienda de euskal herria bildu

una vez más una vez agotada la vía judicial ante los tribunales del estado para que puedan explorar iniciar la vía judicial ante el tribunal europeo de derechos humanos las victimas cuentan en este empeño con el apoyo del ayuntamiento de vitoria gasteiz la diputación foral y las juntas generales de araba

para en colaboración con la asociación buscar justicia en instancias internacionales y en este camino sería importante que cualquier documentación clasificada que pudiera

para que nosotros podamos hacer memoria con toda la verdad aunque esa esperada justicia no llegue que nosotros seamos capaces de construir nuestra memoria basada en la verdad en toda la verdad en cualquier caso sabemos que aunque hagamos esta petición al gobierno de españa

que permite al gobierno de turno hacer lo que quiera respecto a la desclasificación de documentos han pasado cincuenta años desde la aprobación de esta ley y cuarenta desde su reforma puntual creemos que procede ahora abordar como parte del proceso evolutivo natural de toda regulación

consustancial al principio democrático que fundamenta y debiera de regir nuestra sociedad

duerme el sueño de los justos bloqueada por el tándem pp ciudadanos es decir dice el señor barrio que aquí no pueden y allí no quieren con lo cual

como estaba no soy optimista respecto al resultado ni de las consecuencias de esta proposición no de ley ni de la vía judicial hasta ahora las víctimas del tres de marzo se han topado tanto con la pared de la justicia como con la pared política que les pretende negar su propia condición de víctimas

serían suficientes para dejar de lado este vía crucis judicial por qué es tan complicado admitir los errores estuvo mal fue injusto

es verbalizarlo es tan difícil realmente lo hizo cameron como decía la señora larrion con el domingo sangriento lo hizo la república federal

es tan complicado reconocer que estuvo mal que fue injusto es tan complicado es cuestión de voluntad política nada más o a la vista de los hechos nada menos en cualquier caso soy optimista no respecto al futuro de esta proposición no de ley

pero soy optimista porque creo que aunque poco a poco estamos avanzando en la construcción de una sociedad

de reconocimiento y de reparación de todas las víctimas una sociedad comprometida por tanto con el rechazo a cualquier vulneración de derechos humanos desgraciadamente la justicia no está en nuestras manos la reparación en parte sí pero lo que sí están en nuestras manos es la memoria creo que vienen al caso

leída en el funeral de las víctimas del tres de marzo pero el dolor que se expresa sobre todo en el silencio debe encontrar también una voz

para que se sepa que las cosas ya no son como antes de estos hechos y para que las cosas no sean nunca jamás para ninguno otro lo que ahora han sido y son para nosotros

carmelo barrio no sé en qué parte de esta iniciativa hay una falta

decisiones de ningún gobierno nosotros le pedimos una cosa a un gobierno actual eso no es ninguna falta de respeto por las decisiones que tomen es decir nosotros creemos

hacer esto nosotros le décimos esto y no nosotros este parlamento se lo va a decir eso no es no respetar las decisiones de un gobierno

que es otro debate y creo que la han presentado porque es otro debate a mí también me puede aparecer muy bien que haya que reformar esa ley de secretos oficiales pero mientras eso llega

le ha dicho de momento porque no llega también mientras eso llega la iniciativa que nosotros traemos es perfectamente realizable y por eso nos parece interesante proponer en este parlamento porque este parlamento pueda hacer muchas más cosas que legislar

las funciones de un parlamento sea diferente y para nosotros las funciones entre las funciones de un parlamento también tiene que ser la de

e iniciativas que permitan los parlamentos sean cajas de resonancia de reivindicaciones y luchas justas por lo tanto más allá de que el gobierno de madrid nos vaya a decir que no a esta iniciativa como ya sabemos el gobierno de mariano rajoy y quizás

yo no lo niego más allá de eso a nosotros nos parece oportuno traer aquí iniciativas que como digo puedan hacer de esta cámara también una caja

con su permiso desde el escaño señora presidenta pues yo le digo al señor hernández también lo que le decía antes yo he presentado

creo que está en el marco de lo que se pide que desclasificación de documentos no sé si oficiales o documentos en poder de la administración del estado que debe ser en el marco de la reforma esa que está en marcha que bueno debe de tener algunos

en marcha pero bueno algún procedimiento de prórroga de enmiendas pero bueno supongo que

esa reforma de esa ley de secretos oficiales pues abordar el tema de la desclasificación en general de los documentos

yo quiero decirle también que ese es el sentido yo tengo que entender que tengo que preservar la actuación y las decisiones del gobierno en ese marco y en el marco

no voy a votar a favor desde luego de su iniciativa y por lo demás decirle que ojala se desclasifique cuanto antes le vuelvo a decir que como ciudadano como vitoriano como parlamentario yo también tengo interés en conocerlo yo he conocido aquí estudios muy importantes efectivamente

la actuación de los tribunales fueron insatisfactorios absolutamente fueron decisiones de los tribunales insatisfactorios otra cosa fue la aplicación

un proceso de transición en este país pero por otro lado también tenemos que decir que en honor la verdad la verdad también estaba ahí ha habido ejemplares contribuciones a la verdad por parte de los departamentos de historia de nuestra universidad o por parte de institutos en historia que algunos de ellos han servido de base a trabajos parlamentarios en esta cámara así que en ese sentido por ahí también podemos ver

la señora larrion ahora se preocupa

de víctimas del terrorismo se debe preocupar del centro memorial no sé si será del edificio o de qué será exactamente de lo que la señora

es de las víctimas del terrorismo se preocupa de ese sitio de ese espacio pero ella no ha condenado

o sea que es una paradoja que en un debate tan serio como este la señora larrion frivolice tanto muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

señora romero si en esto nos vamos a poner muy fácilmente de acuerdo

para todas y en todos los lugares aquí están los pasos aquí están los resultados y eso es lo que vamos a hacer creo que esta es la parte más sencilla de todo

o cien veces y eso es donde vamos a estar señor barrio

por qué no ha tenido el valor de venir aquí y decir no vamos a votar a favor de esto

si sabemos que eso es lo que está detrás porque cuando ha dicho el señor grajales con toda la razón también que ha habido un acompañamiento

las juntas generales de álava se ha votado se ha acordado y se va hacer un acompañamiento a las víctimas del tres de marzo sin su voto

yo era concejala en el ayuntamiento cuando el concejal maroto también pidió directamente a las víctimas del tres de marzo ustedes eso es lo que hacen fueron ustedes también cuando la asociación del tres de marzo fue a europa los que

porque no van a hacer esa labor porque tienen un discurso aquí y tienen otro discurso en madrid porque ustedes tienen intereses aunque sea porque fue uno de los responsables el fundador de su partido el señor fraga iribarne por lo que ustedes quieran pero díganlo

sigue teniendo un discurso en el que no van a reconocer el tres de marzo o desde luego no van a hacer nada porque evidentemente hay grabaciones se hicieron grabaciones se conoce lo que ha pasado

de todos los que están en sus filas y que tuvieron responsabilidades con aquellos hechos esa también es parte de la verdad y eso es lo que muchas veces la asociación del tres de marzo les está pidiendo y quizás yo no lo he dicho correctamente en mi discurso

esas son las palabras lo que hacía la asociación del tres de marzo que dice de ese centro memorial del que les han excluido a ellas eso es lo que ustedes han hecho y además por eso

algo que tiene que ver con la reforma de la ley cuando todos sabemos que lo que ustedes no van a hacer es precisamente colocarse

justicia verdad y reparación para el tres de marzo

desde el escaño señora presidenta en primer lugar para aprovechar

con respecto a estudiar la proposición de ley

relativa a los efectos oficiales y pedir también que levanten el veto junto a

proposición de reforma de la ley de memoria histórica en la que se establece la comisión de la verdad presentada por el partido socialista y que también procura o pretende

sea del tipo que sea y poder dar esa verdad al menos

otras muchas víctimas que aún permanecen enterradas

y sin señas por toda la geografía española porque nadie se ha preocupado ni de darles verdad

el reconocido enterramiento donde deben y ahora que se habla tanto de olvido yo como no soy muy religiosa me quedo mejor

grajales que diga que las víctimas de todas las violencias de sufrimientos

los recuerdos atroces y de maravilla quebrarán los barrotes de fuego arrastrarán por fin la verdad por el mundo y esa verdad es que no hay olvido nunca habrá olvido gracias

que no le ocupa a este pleno pero en cualquier caso sí le recomiendo que se lea la homilía conjunta de los ochenta sacerdotes del

que yo cite a borges cuando decía que el pasado es indestructible

y una de las cosas que vuelven es el proyecto de abolir el pasado y yo no soy un experto como muchos de ustedes

en esto de la memoria no porque no la tenga no porque no la trabaje me refiero en las teorías y en la construcción de la memoria pero según tengo entendido

de tres modelos diferentes una que mira hacia el pasado basada en eso que llaman el sincretismo memorial

como una fusión de todas las memorias que como resultado de ello todo se diluye y aquí no ha pasado nada otra

la memoria al contrario y una tercera mirada que está basada en el pluralismo memorial aquella que concibe el pasado como la suma

en un diálogo democrático en una memoria en la que debe hacerse sitio

pero siempre con una condición reconocer qué es lo que estuvo mal reconocer qué es lo que fue injusto

si cogemos los últimos ochenta años hay quien utiliza la primera para una etapa la segunda para el otro y al revés y yo creo que ya es hora que en esta sociedad aceptemos acertemos mejor dicho en asumir de una vez por todas la tercera y entre todos seamos capaces de reconstruir una memoria en la que todas las víctimas tengan su espacio a nosotros también señora larrion nos preocupa y mucho

del terrorismo y de sus actuaciones en euskadi esté haciendo sin contarse suficientemente

que existen en esta sociedad y también sin contar con las instituciones vascas no tenga cuidado que pelearemos porque esto

en cualquier caso señor barrio no le voy a contar las cuestiones tan curiosas que derivan de cómo está estructurada la actual ley de secretos oficiales cuando tenemos documentos clasificados

a que nos ataquen los piratas berberiscos le debemos dinero

es de que no tiene ningún sentido porque no lo tiene en ningún país de nuestro entorno es que esté en manos del gobierno de turno más allá de estos parámetros decidir qué se puede y qué no se puede enseñar

lo lógico en países en fin digamos con trayectoria democrática de más de cuarenta años es que

tenga un periodo de exposición concreto y a los veinticinco a los treinta a los cuarenta pueda salir entonces

a usted directamente como decía como ciudadano como vitoriano y como parlamentario que apele a su grupo parlamentario que efectivamente es donde reside la capacidad de hacerlo para que en aras a que se esclarezcan definitivamente los hechos del tres de marzo y otros en la larga historia

desbloqueen de una vez la tramitación de esa ley porque si no en fin nos quedaremos